bueno buenos días a todos los presentes señor lehendakari vamos a ver nuestro grupo quiero anunciar que va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley y por qué miren

un lenguaje verdaderamente duro por qué vamos a votar en contra porque consideramos que esta ley es innecesaria

porque esta ley perdón esta proposición de ley encontramos que es discriminatoria

encontramos que es también y perdonen la palabra porque es dura liberticida

encontramos que esta ley igualmente es chantajista chantajista y probablemente para terminar es ilegal

que me extienda en estos temas por qué es innecesaria vamos a ver yo

que desea aprender euskera en estos momentos y que no lo pueda hacer porque tiene

y si la encuentran les reto a demostrar

tiene conocimiento de todas las subvenciones las posibilidades

que en estos momentos normativamente existen para el transporte por ejemplo vamos a poner a una persona que esté con un muy bajo y es que no pueda

dan subvenciones que no pueda pagar la matricula del euskaltegi que no tenga dinero para libros

y es innecesaria también porque déjenme que les dé unos datos

sobre las matriculaciones y he elegido una las matriculaciones en primaria este año se han matriculado en primaria ciento treinta mil novecientos treinta y dos niños de esos ciento treinta mil novecientos o sea

en el modelo a se han matriculado cuatro mil ochocientos lo entendemos no de ciento treinta y nueve mil cuatro mil ochocientos en el modelo b sube de ciento treinta y uno mil prácticamente

se han matriculado noventa y ocho mil setenta y cinco niños

es el elegido por ampliamente más de la mitad de la población para

en total libertad porque aquí una de las palabras claves que tenemos

entonces es una ley innecesaria innecesaria

además es discriminatoria por qué lo décimos porque aunque en el título hablamos del derecho

pero claro para tomar posesión lo tendremos que leer en el articulado dicen que ese derecho solamente se considerará alcanzado cuando la población contenga un be dos es lo mismo que decir que hasta que no tengas un be dos

y qué pasa con todas las personas que hablan euskera

o un euskera no totalmente asimilado no llegarían al be dos me van a decir que no son euskaldunes

y que hablan parte de su intervención en euskera y que no tendrían un be dos

ni de risa es decir está discriminando entre los que son euskaldunes y los que no y entre los que

pues hay mucha gente que habla normalmente en euskera yo me estoy acordando de mi suegra que cuando decía

litzaizkidake pues siendo de caserío

se me moría de risa y nunca supo bien castellano pero claro como no domines el litzaizkidake eta abar no pasas el be dos o sea que mi suegra murió sin ser euskaldun fantástico

pues digo por lo siguiente usted sabe que en esta ley se plantea que todos los que lleguen

tendrán que ser escolarizados en las dos lenguas les voy a decir dónde está exactamente está

para elegir el modelo no habíamos quedado en eso la palabra es

pues no el que viene de fuera luego hablan ustedes de discriminación

no tiene posibilidad de elegir no tiene que ir al modelo quinientos y se le exige que saque un be dos

un caso la verdad que me conmovió profundamente cuando fuimos

un niño ucraniano que tenía un expediente magnífico estaba detectado como de altas capacidades de diez años creo que tenía

y nos contaba la profesora que se pasó todo el año llorando

como un niño de sobresalientes y de dieces un año entero llorando dicen que solo conseguía sacar la cabeza en matemáticas

las matemáticas tienen su propio lenguaje y lo entendía ese niño

al año siguiente desapareció del colegio no sé qué ha pasado con él claro un año entero llorando

y luego es una ley chantajista porque lehendakari me tengo que dirigir a su grupo

como jefe del ejecutivo no sé si habrá leído la disposición final

una vez publicada en el boletín oficial del país vasco el día en que se aprueben los próximos presupuestos generales de la comunidad autónoma vasca como esto no salga usted no va a tener presupuestos esto es un chantaje es una ley que dice no no

esta se aprobará pero tendrá que ir publicada en el mismo boletín en la que se aprueben los próximos presupuestos generales de la comunidad

porque es que hay otro punto el seis punto dos

para poder obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria o sea que el que no dé el be dos

yo no puedo creer que si tú has terminado todas tus asignaturas bien si no sacas el be dos te nieguen el título de eso te nieguen el título de eso y mire

pero esto es un chantaje porque además otra de las disposiciones que hace es decir que todo lo que hemos normativizado hasta ahora en euskera queda borrado

quedan derogadas todas las disposiciones que contradigan lo dispuesto en esta ley sean del mismo rango o de rango inferior

a cuarenta años de esfuerzos para empezar de cero desde esta ley y ahora me voy a dirigir al grupo socialista ustedes van a tragar por esto

todo el mundo nacionalista y no nacionalistas aplaudió fue que cuando una persona termina

ya no tiene que probar nada pues eso se lo lleva por delante y me dirán ustedes y es cierto

el dictamen de aprobación de la tramitación de esta ley de manifestación del criterio del gobierno en relación con la toma que es positivo y ustedes aquí hacen una enmienda a la totalidad prácticamente no hay un solo

se presenta que no esté enmendada en ese dictamen positivo y me dirán bueno es que se puede hablar de todo hombre de todo no se puede hablar o sea no se puede hablar de negarle a un niño

porque no da el nivel be dos hay cosas conceptos básicos de los que no podemos discutir de los que no se puede discutir ustedes no discutirían sobre si las mujeres son inferiores o no o no discutirían sobre si hay razas superiores o inferiores o no discutiríamos sobre

hay cosas que no se discuten y no se pueden discutir sobre si un niño

pero que no ha dado el nivel be dos le podemos negar el derecho a su titulación

en su dictamen hace una enmienda a la totalidad

se puede hablar de destruir lo que hemos construido en cuarenta años se lo recuerdo

todo lo que vaya en contra de esta ley todo queda derogado y prácticamente

es que derogan todo lo que se ha hecho hasta ahora entre otras cosas lo que en la legislatura lópez se aprobó pero se puede hablar de todo

por qué no miren lo de me acuerdo cuando el lehendakari ibarretxe decía por qué no

ha traducido a a quién hace daño y que

por qué no hay que contestar por qué sé en qué mejora

sino en qué mejora lo que ya tenemos esa es la pregunta la pregunta por qué no o a quién hace daño es la pregunta de un niño que se dedica a destrozar un juguete carísimo

no no hay que ir para adelante no para atrás y por tanto la pregunta es en qué mejora en qué nos beneficia a todos esa es la pregunta de verdad yo desde lo del por qué no

adoptado por el señor egibar y por la señora ubera digo pero vamos a ver

si esas no son las preguntas las preguntas son cómo vamos hacia adelante en qué nos mejora toda la vida no a quién hace daño bueno hacer daño esto hace daño a mucha gente señora ubera entre otras cosas a la gente que no saque un be dos

porque estos señores están dispuestos a hablar y están dispuestos a hablar por el chantaje que supone que ustedes les digan y esta ley se aprobará en el mismo boletín que los presupuestos generales de la comunidad autónoma que es lo mismo que decir si no se aprueba esta ley aquí no hay presupuestos

es una cosa yo no la he visto en la vida no la he visto en la vida la verdad esta ley

cuando toque y los presupuestos generales de la comunidad autónoma seguirán su camino y cuando se aprueben se aprobarán y se publicarán pero usted se da cuenta señor lehendakari que le han juntado las dos cosas

y señor lehendakari no me corresponde a mi porque soy una humilde parlamentaria de a pie pero debo decirle que

a lo que le marca el grupo de eh bildu muchísimo en esto

muchísimo muchísimo sí sí tuvimos un plan ibarretxe

del primer borrador quitaron lo de nacionales y ciudadanos y ahora ha vuelto a aparecer lo había metido eusko alkartasuna y ahora ha vuelto a aparecer entonces yo le pido por favor señor urkullu que se sacuda

que le están haciendo probablemente parte de su partido pero también estos señores y no se avenga a discutir esta ley no se avenga a discutir esta ley vamos a ver y luego volviendo a esta ley lo último ya esta ley

tiene como objetivo resolver un problema que está detectado mire la comisión de educación tiene un mérito grandísimo porque en la primavera pasada

se convocó a veinte o veinticinco especialistas más o menos en la situación del euskera para que vinieran a hablarnos le digo que tenemos mérito porque fue una cosa muy larga

atendió con gran atención cuál es el problema del euskera y ustedes lo saben y es que el euskera no se habla en la calle o no se habla tanto como se debiera hablar y ese es el problema real que tenemos y eso no se arregla

porque ahora hay infinidad de niños que tienen que saben vamos que llegan al be dos y que lo usan parcialmente porque somos una comunidad bilingüe

y ahora nos decía la señora ubera no porque queremos que todo euskal herria

pero que somos una comunidad bilingüe que esto lo que está haciendo es expulsar al bilingüismo lo está expulsando y lo que empieza como en el título lleva la palabra derecho al final se convierte en obligaciones obligación de sacar el be dos en euskera

hayas tenido unas calificaciones fantásticas obligación para los grupos que apoyan al gobierno de

porque se va a publicar el mismo día que se publiquen los presupuestos generales de la comunidad autónoma y miren ahora me voy a poner en el mejor de los escenarios pero aquí hay personas que viven el asunto del euskera con un nivel de angustia que yo me siento solidaria con ellas por lo que sufren yo recuerdo algún parlamentario de este lado por el que siento

pero es que el euskera es un idioma extranjero en muchas áreas en bastantes áreas de euskadi fue como si le hubiera dado una puñalada en el corazón claro

es el fuero de avellaneda no es el fuero de

en las encartaciones hace siglos que no se hablaba euskera entonces el euskera allí es un idioma extranjero lo mismo pasa en grandes partes de álava y esto es una realidad

no solo por recuperar el euskera sino por implantar el euskera en muchas zonas en las que hace siglos y siglos y siglos que no se habla

que viven con tanta angustia el euskera y lo que se está perdiendo y que son personas de buena voluntad otras

vamos como otra cualquiera pero hay muchas personas que de verdad lo sienten con gran angustia y yo les diría que no se preocupen que los vascos siempre vamos a ser ya me acuerdo cuantas veces le he oído decir en esta tribuna a la señora ubera

a todos los etorkinak a todos los inmigrantes para que se unan a las fuerza

yo digo y digo pero por favor pero no se preocupen sobreviviremos y saben por qué sobrevivimos

no somos una comunidad lingüística ningún país ningún país democrático basa su cohesión

en una lengua que yo sepa en suiza se hablan tres lenguas el italiano el francés y el alemán y son un solo estado y que yo

la misma lengua alemán y no por eso son un solo estado no somos una comunidad

somos una comunidad jurídico política eso es lo que somos y eso es lo que nos da nuestros derechos

el ser una comunidad jurídico política la lengua es un instrumento no un ídolo y desde luego nuestro grupo

no está dispuesto a sacrificar ante ese ídolo no está dispuesto a sacrificar

en ejercicio de su libertad no está dispuesto a sacrificar ante ese ídolo

que se han matriculado en modelo b y que quizás no alcancen el be dos no está dispuesto a sacrificar ante ese ídolo

setenta y cinco niños que se han matriculado en modelo quinientos pero que puede ser que no consigan el be dos

a todos esos euskaldun zaharrak que hablan en euskera pero que no darían el be dos y desde luego no estamos dispuestos a sacrificar la dignidad de esta cámara aceptando ese chantaje que esta ley se aprobará

la ley de los presupuestos tengamos dignidad tengamos dignidad entonces como les digo nosotros consideramos que esta ley si algo hace es perjudicar al euskera porque echa por tierra todo el trabajo de cuarenta años que se ha hecho perjudica al euskera porque barre dice que quedarán anulados

entre otras cosas lo que se aprobó en la legislatura del señor lópez y además es que encima creemos que no es ni legal no creo que le puedas negar a un niño el título de eso porque no ha dado el be dos en euskera es que no me cabe en la cabeza

los partidos que apoyan al gobierno y sobre todo el grupo socialista que no entiendo qué pinta aquí pero vamos perdónenme eso debe de ser cosa mía sí

les voy a decir una cosa sobre si somos libres o no somos libres no se puede hablar y sobre los chantajes no se puede hablar

mire señora ubera le voy a contestar sabe por qué quizá mis intervenciones por lo menos procuro que no pesen demasiado en el ánimo de esta cámara

porque no quiero que esta cámara se convierta en lo que hemos visto que se han convertido otras cámaras en españa pero usted ya ha dado el primer paso diciendo que mis argumentos son fascistas yo nunca le diría eso a usted esa es la diferencia entre ustedes y nosotros usted ya ha empezado a dar el primer paso

yo nunca lo haré es más nuestro grupo cuando defiende una postura

que personalmente nadie se sienta herido y creo que ustedes tienen buena prueba de ello pero usted ya empieza a señalar con el dedo de fascista para lo cual por cierto pido el amparo de la presidenta ya somos fascistas

nos han llamado muchas cosas pero ya empezamos por ese camino ya empezamos y me pregunta usted qué tipo de sociedad quiero yo pues yo quiero una sociedad en que la gente sea libre

de elegir dentro de lo que aparece en los marcos normativos y legales

no tengan que sacar el be dos para recibir su título de enseñanza secundaria obligatoria

y no obligue a los inmigrantes a estudiar en las dos lenguas que ellos también puedan elegir

el gran esfuerzo que ha hecho esta sociedad libremente no obligadamente libremente para recuperar el bilingüismo el bilingüismo yo quiero una sociedad

esté perdiendo el tesoro que tenemos también de nuestra segunda lengua que como usted sabe el castellano para ustedes que como usted sabe en el último consejo escolar nos dijo la presidenta que se está detectando

faltas de sintaxis carencia de vocabulario en castellano

el consejo escolar vasco es un caso distinto pero como vamos por el mismo camino

donde el castellano no se habla bien salió ayer la noticia y la admisión

yo quiero una sociedad donde los euskaldun zaharraz sean

sí pero no lo hablas bien porque no tienes el be dos y donde se puedan seguir riendo porque alguien use cosas tan complicadas como

como se reía mi suegra yo quiero nuestro grupo perdonen que

de plural mayestático yo quiero nosotros queremos una comunidad donde el que dirige esa comunidad el lehendakari

pacta no para imponer nada sino para conseguir una mejor vida para todos nosotros esa es la comunidad que yo quiero y le digo que es un plural mayestático que nuestro grupo quiere y vamos a seguir en ello

con mucha facilidad a arrinconar y a eliminar

llamándole fascista usando métodos que afortunadamente ahora ya no se usan

ridiculizándole y llamándole fascista y diciendo que su pensamiento es fascista pero a eso estamos acostumbrados a lo que no estábamos acostumbrados es

el grupo nacionalista vasco le ría las gracias no defienda la dignidad de todos los que estamos aquí y de nuestros argumentos

no el sitio donde diga donde se llame fascista a esos argumentos

cosa que nosotros no hemos hecho con ustedes ni tampoco estábamos acostumbrados

no sabemos por qué con este proyecto de ley es que nos parece

nuestro grupo no va a responder igual yo espero que todas las intervenciones de nuestros grupos
pesen personalmente ni ofendan a nadie y esa es la línea en la que vamos a seguir muchas gracias eskerrik asko de bengoechea

ze gauza ze gauza borja quejarme de lo que considero oportuno

más allá de la consideración que la señora juana de bengoechea le ha hecho

ez daukazu hitza honi buruz más allá de esto quiero quiero decirle permítame que me explique señora presidenta

ejercer un derecho parlamentario cuando ni tan siquiera la presidenta me permite ejercerlo
más allá de que otros parlamentarios no me lo permitan no a ver borja borja sémper jauna déjeme que me explique y a lo mejor no es apropiado

me parece relevante lo que voy a decirle permítame que se lo exprese
no tiene nada que ver con lo que la señora bengoechea se ha quejado bueno ba beste momentu batean hitz egin beharko dugu es que está relacionado con el punto

lo que quiero decirle señora presidenta es que difícilmente sus llamadas al orden son recibidas por esta cámara

al menos la imparcialidad en los gestos en las risas
y en los comentarios bueno mesedez ba guri esateko y hay un miembro de la mesa concretamente el señor iturrate que no deja de mofarse continuamente de las intervenciones de hacer gestos y aspavientos y los miembros de la mesa tienen la obligación

la seriedad y el rigor si no difícilmente podrá usted ordenar
y llamar callar al resto del parlamento mesedez sémper jauna lehenengo aldia deitu dizutena ordenera mesedez

euskarri y las tecnologías que se utilizan desde estos centros es interesante aclarar que a pesar de que es una herramienta informática buena

no es muy difícil que ese sistema se caiga lo dije también en mi interpelación la última vez creo hace dos fines de semana y cuando ese sistema falla se utiliza la herramienta

porque no hay otra y porque aun siendo un programa mucho más antiguo se implantó en mil novecientos noventa y seis es mucho más seguro tanto es así que las centrales de la ertzaintza nunca se pasaron al euskarri y siguen funcionando

por lo tanto también sería interesante preguntarnos si ante estas situaciones existen algún plan de contingencia común entre sos deiak y emergencias para hacer frente

nosotras creemos que no por otra parte recordemos que el consejero nos decía que el factor de conocer el entorno no tiene importancia porque tecnológicamente está resuelto y tenemos también serias dudas no sé si recuerdan el ejemplo que expusimos en el debate de la interpelación sobre la posibilidad de que en diferente municipios o ciudades existan calles con el mismo nombre

pero lo que sí quedó claro a nuestro entender es que el conocimiento del entorno facilita más rápida una atención mejor porque además es más fácil conocer los espacios del centro más cercano que el de los tres herrialdes en global

hitzez hitz el porcentaje de trasplantes que salen del donante en asistolia es menor del quince por ciento bueno

egin dezala es fundamental que las personas que trabajan en ese servicio aporten su

bien su trabajo hay que escuchar sus propuestas hay que tenerlas en cuenta porque si no cualquier estudio que se pretenda realizar no va a ser del todo fiable

que nos dejó un poco preocupadas se preguntaba si entre los motivos para cambiar de modelo debería de prevalecer la integración de los profesionales diferentes versus

laborales nosotros décimos por qué hay que anteponer unos criterios a otros por qué no es posible tomar en consideración todos esos factores y muchos más

entre los ciudadanos ante el anuncio de la posible unificación de los

distribuidos en los tres territorios históricos en un único territorio en bizkaia y concretamente concentrarlos en

edo eztabaida hau inportantea dela momentu honetan en el último pleno de control este grupo formuló una interpelación dirigida al consejero de salud

en donde hicimos una mención especial a la cuestión de las emergencias y del servicio de emergencias de

engloban el conjunto de servicios operativos ordinarios que de forma permanente y con funciones específicas intervienen en donde se produce una emergencia por eso hablamos de trescientos sesenta y cinco días veinticuatro horas

esenciales estamos hablando de servicios que intervienen en situaciones de emergencias en situaciones vitales

estamos hablando de salvar o no salvar una vida y por lo tanto características innatas a estos servicios

en la respuesta y también la toma de la decisión adecuada en relación al recurso o las decisiones correspondientes que haya

el servicio de emergencias lo componen emergencias osakidetza las de los ayuntamientos y diputaciones

en su momento se apostó por un modelo de recursos conjunto entre seguridad

en su momento interior y osakidetza eta larrialdi

coordinado de recursos de diferentes recursos de emergencias que tienen que actuar indudablemente de una manera eficaz ordenada y coordinada

por un modelo de tres centros en cada uno de los territorios y creemos que en su momento fue una buena decisión sí que es cierto y como nos explicó

que trae hoy el origen de esta moción que en su momento se estableció una plataforma única telefónica soporte al sistema vasco de emergencias que engloba el conjunto de respuestas procedimientos recursos protocolos que existen

en todo el territorio de la comunidad autónoma del país vasco voy acabando porque creo que hay un acuerdo y es un acuerdo muy claro en relación

los grupos que apoyan al gobierno el partido nacionalista vasco y el partido socialista y también

egiten du azkenean akordio hau aho batez hartu dela nosotros planteamos en nuestra enmienda la necesidad de realizar un estudio

previo a la toma de cualquier decisión y en ese sentido mostramos nuestra satisfacción porque la realización y el instar al departamento de salud al gobierno vasco mejor dicho

en la enmienda de transacción como digo acordada por todos los grupos creemos que es importante que se realice un estudio previo a la adopción de cualquier decisión de ese estudio que nos tiene que dar una radiografía concreta de cómo está la situación de emergencias en euskadi se tomen las medidas que sean necesarias para la mejora

medidas necesarias que pueden ser en cualquier ámbito y sobre todo nosotros hacemos una especial referencia a medidas que tienen que ver con que se de esa atención rápida inmediata

disponibles en este momento medidas que tienen que ver con la necesidad en su caso incrementar los recursos

disponibles en este momento y también medidas que tienen que ver con que se de esa atención rápida e inmediata por lo tanto nosotros satisfacción porque

plasmado en un punto específico que este proceso

del gobierno en relación a la posible unificación de los centros coordinadores de emergencia y el traslado de los centros actualmente existentes

quede paralizada cualquier decisión en torno a esta cuestión hasta que no tengamos un estudio concluyente en relación a cómo es la situación la radiografía de la situación de emergencias y las medidas que en su caso haya que tomar

en ningún momento pueden suponer una merma en la calidad del servicio y nosotros

ese anuncio tiene que quedar absolutamente paralizado y que esas intenciones del ejecutivo no se pueden plasmar en una

como así parece que era la intención de este ejecutivo besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido

gracias presidenta y buenos días bueno yo creo que este asunto que ya

hemos firmado todos los grupos que teníamos enmienda tampoco creo que haya que repetir más de lo que ya han dicho las anteriores portavoces puesto que hemos sido capaces de llegar a un importante acuerdo este tema no es la primera vez que se trata en este parlamento ya explicó como

planteó las explicaciones oportunas algunas de las apreciaciones que hacía la señora blanco y entendemos que dio las respuestas necesarias a las dudas planteadas que es hoy lo que

que yo creo que era algo que preocupaba a los partidos de la oposición y por otro lado se reconoció la necesidad de hacer ese análisis riguroso con eficacia y eficiencia respecto

y que desde un comienzo planteábamos los dos partidos que sustentamos al gobierno la preocupación desde luego para el grupo socialista y entendemos que para el gobierno es el modelo de atención integral que va más allá del número de centros y dónde puedan localizarse

no es la primera ocasión que se plantea la necesidad de reflexionar y de hacer un importante

que por otra parte es lo que debemos garantiza y además hay dos departamento implicados

del éxito del asunto por otra parte y no menos importante es la labor y la importancia de los trabajadores uno de los aspectos que ha señalado la señora blanco y que ya hizo en la presentación de la interpelación

la importancia y la opinión del colectivo y este aspecto fue además reconocido en el pleno por tanto se van a tener en cuenta sus opiniones y sus aportaciones tal y como se recogen de forma literal en el texto firmado

que es importante reconocer este acuerdo en un asunto de salud puesto que llevamos una trayectoria en el que la confrontación y el desacuerdo es lo que protagonizaba los temas

una votación por unanimidad en algo tan importante como las emergencias en euskadi no existe una decisión tomada que vaya a ponerse en marcha ya entendemos que lo importante es el modelo como he dicho más allá del número de centros es importante y fundamental tener en cuenta la opinión y el posicionamiento de los trabajadores

y habrá que analizar las alternativas y las consecuencias de las mismas por tanto debemos felicitarnos por el acuerdo reconocer la importancia del asunto la preocupación del gobierno por el mismo y la necesidad de trabajar escuchando a los colectivos implicados por tanto creo que en un tema de unanimidad como este con todo lo que nos cuesta en este departamento llegar a ello creo que no debiéramos añadir mucho más nada más y muchas gracias

eta zerbitzuaren kalitatea el consejero nos traslada con la más absoluta de las claridades una respuesta no hay ninguna decisión tomada referida a los centros coordinadores de emergencias de osakidetza

lo que hay es una intención y la intención es realizar un análisis riguroso sobre la cuestión es por ello que al presentar ayer nuestra su moción señora blanco los grupos que apoyamos al gobierno recogíamos en nuestra enmienda esa idea sustancial necesidad de realizar ese análisis riguroso

recogíamos otras dos ideas es objetivo ahí están en nuestro escrito de ayer la segunda idea es que ese análisis sea la base para tomar la decisión más adecuada y la tercera idea es que la brújula de ese estudio sea la perspectiva de eficacia eficiencia y calidad de servicio

que el servicio debemos observar que el servicio cumpla los objetivos que pretendemos conseguir eficacia que en ese cumplimiento lo consigamos o que ese cumplimiento lo consigamos

y que lo cumplamos con la más alta de las calidades además de las ideas nucleares que compartimos con el consejero

compartimos con él una idea motor en cualquier ámbito de responsabilidad de su responsabilidad o de cualquier otro consejero en cualquiera de los servicios en cualquiera de los procedimientos en cualquiera de los protocolos en cualquiera si analizamos el detalle es posible seguramente encontraremos un margen de mejora encontraremos la posibilidad de avanzar

de un consejero analizar determinar posibilidades de mejora diseñar acciones y aplicarlas y el servicio de emergencias no es una excepción

cuántas organizaciones conoce usted que no hayan realizado ninguna modificación sustancial en un periodo tan largo de tiempo en treinta y cinco años

señora blanco más allá de la escenificación que en esta tribuna podamos hacer cualquier de nosotros

o que extractar las síntesis de su intervención además de la determinación del objeto que le reconozco le reconozco su laboriosidad

que es compartida resumiría su interpelación en una frase suya y le cito

zenuke en resumen a mi entender comparte

comparte la idea motor de que pueden existir ámbitos de mejora y además comparte esa secuencia de análisis planificación debemos pensar

su interpelación diciendo digamos si con la decisión que han tomado y han puesto encima de la mesa creen que ante situaciones de emergencia vitales en muchos casos se va a prestar un servicio más ágil más eficaz más humano un servicio mejor si secuenciamos la pregunta y la respuesta

le pregunta al consejero señor consejero por qué han tomado esta decisión cuando deberían haber hecho un análisis riguroso antes de actuar

señora blanco no es así no hemos tomado ninguna decisión a día de hoy nuestra intención es realizar un análisis que no ayude a tomar la decisión más adecuada por eso pero el caso es que esta

se ha convertido en algo un poco más serio moción consecuencia de una interpelación y a mí sinceramente me sorprendió su texto el texto de su justificación y el texto de su moción a ese primer momento de sorpresa tengo que reconocer que después de ese momento de sorpresa y hablando con usted y

el planteamiento por decirlo así me sorprendió menos me gustaría recordar un dato de este servicio durante dos mil diecisiete más de cuatrocientos mil llamadas recibidas más de cuatrocientos mil respuestas rápidas y diligentes

e indiscutible profesionalidad hubiesemos podido dar esta respuesta señor consejero en mil novecientos ochenta y tres pues seguramente no

de acuerdo a la situación a los recursos tecnológicos y a los profesionales

y no tengo duda de que cada vez que entendían que podían mejorar lo hacían

décadas de trabajo compartido que nos obligan a seguir actuando persiguiendo la eficacia la eficiencia y la calidad en el servicio

que nos obliga a valorar y a analizar los mejores modelos de emergencia de nuestro entorno y de fuera de nuestro entorno que nos obliga a perseguir la innovación en el servicio

que cualquiera que sea la decisión que se tome tendrá repercusiones en el servicio

en el pasado pleno de control la necesidad del análisis en profundidad

el detallado estudio de cada una de las alternativas y se sus impactos decía usted en atención sanitaria condiciones laborales

tecnológicos espacios físicos de trabajo y así lo trasladó y lo defendió en su respuesta a la interpelación necesidad

de que desde aquí se impulse de forma conjunta esa es la importancia a mi juicio del acuerdo de hoy el agradecimiento como

de los grupos que persiguiendo ese margen de mejora lo han hecho a través o en forma de acuerdo eskerrik asko eskerrik asko

egun on guztioi mahaiburu andrea legebiltzarkideok ayer en este parlamento estuvimos participando algunas de nosotras en una actividad sobre igualdad

fueron tres horas de intercambio hablaron de sus preocupaciones y propuestas salieron temas como

eskerrik asko la cultura de la violación el amor romántico el respeto de los cuidados pensé en mi adolescencia y en lo extraños que estos temas

al final de la jornada llegamos a la conclusión de que hay muchísimo camino por recorrer

ni se hablaba de ello y eso que como digo hemos avanzado algo me quedó la sensación de que la sociedad está cambiando y que las personas jóvenes no van a permitir un paso atrás ni que las instituciones públicas no estén a la altura

de barcelona el futuro no es machista realmente los principios

avanzan continúan conquistando el sentido común se extienden y se consolidan

de reconocimiento a la contribución del feminismo a la desnaturalización de las violencias

de los cuidados a la crítica de las teorías económicas tradicionales al cuestionamiento de un modelo socioeconómico que genera desigualdades sociales a la conquista de derechos para todas y todos y al desarrollo de conceptos fundamentales como son justicia igualdad

algunas adolescentes ayer se presentaban como feministas

los desafíos que tenemos por delante son muchísimos y las y los adolescentes de ayer

la foto y frases de alguna mujer de gran relevancia en la historia clara campoamor emma goldman virginia woolf

entre otras muchas curiosamente los y las adolescentes de diecisiete años no habían conocido a esas mujeres en su trayectoria educativa un dato que revela

continua omitiendo una parte fundamental de la historia política social económica y cultural de la humanidad una muestra más de la invisibilidad que sufrimos las mujeres así que antes de entrar de lleno a esta iniciativa quiero hacer un recordatorio este domingo veinticinco de noviembre

minerva y maría teresa mirabal conocidas en su actividad política

las hermanas fueron asesinadas por ser mujeres y por ser activas en la resistencia a la dictadura de trujillo es imprescindible recordarlas porque ellas al igual que todas las que he mencionado antes son una parte

que es la genealogía de todas nosotras las mujeres

y de todos y sin ellas nuestro presente sería mucho más difícil sin duda dicho esto que está estrechamente relacionado con la iniciativa que traemos

hoy desde elkarrekin podemos desde nuestro grupo parlamentario

machistas el objetivo es que ocupen un lugar central en la agenda política mejorar las políticas de prevención atención protección y reparación

impulsar cambios en la forma en la que se aborda esta vulneración sistemática de los derechos humanos hacia las mujeres con este fin nos parece muy importante que hablemos de todas las manifestaciones de violencia que sufrimos las mujeres desde las más sutiles como el chiste

la palabra de una mujer hasta la irreversible el femenicidio

incorporar la interseccionalidad en nuestros análisis debate e iniciativas digo esto porque las mujeres no somos un todo homogéneo

y las violencias machistas se materializan de diferentes formas en nuestras vidas todas sufrimos violencias machistas pero no todas de la misma forma

en nuestros recursos personales en nuestras redes familiares en nuestras creencias expectativas e intereses por lo tanto cada proyecto

combina elementos comunes a todas las mujeres y también elementos individuales elementos muy particulares los segundos son clave para que cada

propio y adaptado a sus necesidades tiempos y fuerzas incorporar la interseccionalidad cuando hablamos de violencias machistas supone reconocer

nuestra tarea y responsabilidad es blindar medidas que den respuesta a las necesidades de todas las mujeres así lo establece el séptimo plan de igualdad entre sus principios orientadores incluye

aunque en el patriarcado las mujeres comparten una identidad de género no responden a una única seña identitaria y continua

pueden ser la lengua la clase la etnia la orientación sexual la identidad de género la edad la diversidad funcional la interseccionalidad implica la propuesta de una acción más compleja e integradora

en la interpelación del otro día el señor lehendakari nos respondía ignorando esta perspectiva interseccional

por ejemplo cuando dijo en el problema de violencia machista no hay edades sobre las que actuar

toda la atención y todo el apoyo sin embargo para que esto sea real y no solo un eslogan

y la situación y necesidades de las mujeres mayores son diferentes

a las de una adolescente de quince años o a una joven de treinta todas pueden ser víctimas de violencias machistas por supuesto todas tienen que recibir la atención y el apoyo pero no todas necesitan los mismos apoyos los mismos recursos y las mismas respuestas para salir adelante

que por parte de los partidos del gobierno hayan comprendido lo que exponíamos en la interpelación al lehendakari y entendido también el motivo de nuestra moción que no es otra cosa que actuar teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres que sufren violencias machistas hoy ponemos el foco en uno de los factores que según los datos está incidiendo en que muchas mujeres se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad y se prolonguen situaciones de violencias machistas en el ámbito

este factor es la edad según datos oficiales publicados por emakunde entre los años dos mil dos y dos mil diecisiete casi el cuarenta por ciento de las mujeres asesinadas por violencias machistas tenían más de cincuenta años

vemos cómo las mujeres mayores son las que menos denuncian sobre todo en el caso de violencias ejercidas por pareja

y cuanto más mayores son menos denuncian apenas hay datos de las violencias en casas residencias espacios de ocio o familiares pocas medidas enfocadas a ellas y no hay medidas específicas

mayores muchas de ellas han sufrido y sufren maltrato durante muchos años

y están atrapadas desde hace décadas en el maltrato bien por un sistema de creencias bien por las dificultades de comunicación en algunos casos

dependencia por motivos de salud o motivos económicos por los defectos más rígidos del proceso de socialización patriarcal

aislamiento y cómo no porque creemos que la propia sociedad todavía no reconoce que las mujeres mayores también sufren violencias

mayores se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y con mayores dificultades para llevar adelante proyectos de vida libres de todo tipo de violencias por todo ello hemos presentado desde elkarrekin podemos esta iniciativa a debate con el objetivo de mejorar las oportunidades de las mujeres mayores a vivir vidas libres de violencias machistas con propuestas y medidas que tocan diferentes ámbitos de actuación y de forma

y reconocer la contribución histórica y actual de las mujeres mayores al desarrollo de la sociedad vasca y a la conquista de los derechos a través de jornadas talleres y al menos dos campañas visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre la existencia de las diferentes formas de violencias machistas que se ejercen sobre las mujeres mayores

en particular desde el ámbito sociosanitario revisando los protocolos de atención que elaboran en el marco del tercer acuerdo que elaborarán en el marco del tercer acuerdo interinstitucional para la atención de mujeres víctimas del maltrato en el ámbito doméstico y violencia sexual

y brindar respuestas adaptadas a la realidad particular de las mujeres mayores así como reforzar los programas de apoyo para la atención y protección a víctimas de violencias machistas hay que tener en cuenta en los procesos de intervención que puede

las dificultades de comunicación en algunos casos mayor dependencia por motivos de salud o precariedad económica y con el fin de recabar toda esta información pormenorizada a este respecto

de dos mil once la autonomía de las mujeres mayores en el país vasco y su contribución a los procesos de empoderamiento y añadiendo como creíamos necesario en esta ocasión un capítulo en el que se aborde

hacia las mujeres mayores otro punto era organizar jornadas de reflexión e intercambio y formación específicas sobre violencias machistas y mujeres mayores orientadas fundamentalmente a brindar herramientas especializadas a los y las profesionales que atienden los sistemas de prevención

machista también pedíamos incorporar en el proyecto de ley sobre violencias machistas todas las medidas que sean necesarias para abordar todas las formas de violencias machistas que sufren las mujeres y también haciendo hincapié en las formas particulares de violencias machistas que se ejercen hacia las mujeres mayores y por último a complementar

profundicen en el conocimiento de las violencias machistas que sufren las mujeres de más edad a partir de esta propuesta de elkarrekin podemos celebramos haber alcanzado

las formaciones políticas y agradecemos el trabajo de todas para llegar a este acuerdo eskerrik asko y para finalizar recordar que este domingo las mujeres volverán a la calle las mujeres volveremos a la calle con motivo del veinticinco de noviembre

en las capitales vascas este año bajo el lema sobre la injusticia patriarcal articulación

a participar en las manifestaciones y actividades que se realizan en los próximos días en todos los pueblos y ciudades de euskadi besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

edo arinago apurtzea toxikoak izan daitezkeen harremanak aunque la violencia de género no tiene edad

maridos parejas cónyuges muchas de ellas trabajaron toda su vida cuidando del hogar sus hijos y sus parejas

a ello contribuye también el mandato patriarcal de la buena esposa

de preservar la unidad familiar un rol que la sociedad reservó con mucha claridad para las mujeres que hoy tienen sesenta y cinco años o más y que fueron educadas en plena dictadura fascista en este momento en el que los cuneteros

en la que los fascistas quieren hacerle el loa a la dictadura quiero recuperar la memoria de las luchadoras antifranquistas de las que lucharon fuera y dentro del hogar a las que se les quiso imponer la doctrina de pilar primo de rivera de la sección femenina a aquellas mujeres que salieron a dar su voto por primera vez aquí en euskal herria desafiando todas las tradiciones que querían mantener a las mujeres en el espacio privado

honelako ideiak zabaltzen zituen besteak beste no hay que ser una niña empachada de libros que no sabe hablar de otra cosa

una intelectual entre mil novecientos treinta y siete y mil novecientos setenta y siete tres millónes de mujeres de entre diecisiete y treinta y cinco años hicieron el servicio social una suerte de mili femenina que suministraba mano de obra barata

barata no gratuita a los hospitales comedores y otras instituciones socio sanitarias ellas decían

a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse proposamen honek

pilar primo de riveraren hitz batzuk zitatzen amaitu nahi nuke todos los días deberíamos de dar gracias a dios

porque si lo tuviéramos quién sabe si caeríamos en la vanidad

pues le vamos a contradecir una y mil veces alboan utzita

esaten zuten no pasarán los que quieren hacernos retroceder no pasarán los que nos quieren calladas y sumisas ez dakitelako oraindik

gracias señora presidenta señores consejeros señores

berriro yo señora etxebarrieta voy a intentar de centrar el debate porque creo que cuando hablamos de estos temas y sobre todo cuando hablamos de combatir la lacra de violencia de género un problema que sufren

asesinadas creo que este problema merece un tratamiento específico y desde luego

hacer una ceremonia de la confusión con discursos que creo que empañan claramente el tema que nos ocupa por otra parte creo que usted tiene

algo más joven que yo y yo de la época a la que usted ha hecho referencia

ningún recuerdo por la edad en la que me tocó

referencias que pueda tener sean de oídas o de los libros de historia que muchas veces

de toda la historia y también de la historia reciente aquí en euskadi

tal vez pero yo desde luego no recuerdo y no sabía que la señora

tuviera doctrina no tenía conocimiento de esa novedad

emakumeen aurkako bortxakeriari buruz hitz egitea la moción que nos trae hoy podemos trata de hablar

sí que yo aquí no tengo una cuestión muy clara y la quiero introducir como cuestión previa a este debate de limitar a partir de qué edad una mujer es mayor señora arana porque

proporcionó el otro día nos hablaba de los datos correspondientes al periodo dos mil dos dos mil diecisiete en el que nos hablaba que un treinta coma noventa y cinco por ciento de las mujeres mayores de o con cincuenta años eran asesinadas no sé si

a partir de los cincuenta años mayor

mayores por lo tanto las equiparamos a las mujeres que son mayores de esta

como decía son muchas las iniciativas que hemos debatido sobre este asunto pero por grupos de forma parcelada por grupos y sobre todo por segmentos de edad y nosotros desde el partido popular

un acuerdo por amplia mayoría y por unanimidad en este parlamento pero creemos más conveniente y se lo digo con toda sinceridad señora

hacer un abordaje un tratamiento de la situación

para combatir la lacra de la violencia de género desde un punto de vista integral global y desde esa visión conjunta que tenemos que tener de la situación de las políticas puestas en marcha para combatir o para la lucha contra la violencia de género desde los ámbitos institucionales en aras

desde esa perspectiva global integral total de lo que es la violencia de género como problema que tenemos

sociedad nosotros presentamos una iniciativa que va a ser debatida el próximo jueves creemos importante que en ese sentido se hable y hablemos y comentemos el compromiso del gobierno vasco en relación a la remisión del proyecto de ley contra la violencia de género creemos importante también

de legislatura y puesto que hemos debatido muchas iniciativas en relación a esta cuestión se haga también una evaluación y un balance

concretas al gobierno que es lo que vamos a tratar en la iniciativa del partido popular como digo se debatirá el próximo jueves

cuestiones pendientes el poder mejorar los protocolos existentes es decir creo que es mejor abordar o tratar este debate no de una forma parcial como hacemos a través de numerosas iniciativas que no tenemos ningún inconveniente sino de una perspectiva como digo

integral y global de este asunto pero volviendo al tema que nos ocupa hoy y hablando de la situación de la violencia que sufren las mujeres yo creo entender que usted ha intentado motivar su iniciativa en relación a la especial situación de vulnerabilidad que pueden vivir

por determinadas circunstancias en algunos casos puede ser así pero también y como le dijo el otro día

tampoco hay que concluir que todas las mujeres

de cincuenta años tengan o requieran una intervención especial yo creo que es importante recordar

hacer una evaluación de la situación existente de la evaluación de los programas puestos

el programa jabetuz dirigido a la formación de los profesionales que intervienen en todo el proceso

y a nosotros nos parecía importante y voy acabando señora presidenta incidir en aquellas

que suponen mejoras en los distintos ámbitos de actuación que entendemos que tienen que englobar cualquier medida que se ponga en marcha en relación al problema de la violencia de género

y entendíamos que su iniciativa original incidía más en los ámbitos de la sensibilización prevención campañas que me parecen importante

una vez que las mujeres interponen una denuncia cuestiones concretas que tienen que ver con la asistencia con la protección con el apoyo y también con la situación de los menores estas cuestiones han sido introducidas en la enmienda de transacción y por eso

acordada por todos los grupos yo quiero finalizar haciendo también una mención o una referencia que desde luego yo

conseguir ese futuro más justo en los que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos los derechos que les corresponden

límite que ponga o que marque la ley y desde luego una sociedad más justa y

todos los instrumentos o mecanismos que sean necesarios para combatir

importante el acuerdo hoy alcanzado pero también tengo que decir que creemos que es mejor hacer un abordaje de este asunto en su globalidad y en ese sentido también esperemos que ustedes traten con cariño miren con cariño la iniciativa que se debatirá

de próximo pleno ordinario de la próxima semana besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido

gracias presidenta y buenos días a todos otra vez

y como decía la señora arana en el último pleno de control las políticas relativas a la igualdad a las violencias machistas a todo lo que tiene que ver con los movimientos feministas

y como ya nos ha anunciado la señora garrido que ya conocíamos también hablaremos sobre el tema la semana que viene podemos afirmar creo sin ninguna duda

la violencia machista y creo que aunque haya iniciativas en las que no logremos una unanimidad como es en este caso

ni la preocupación que todos los grupos parlamentarios de esta cámara tenemos respecto a este tema es cierto por centrarnos en el tema de la violencia machista en mujeres más mayores

y aunque es cierto que hay un mayor número de denuncias también es cierto que las víctimas no descienden sino que no dejan de crecer teniendo en cuenta que el número de mujeres mayores de cincuenta años también es verdad

es importante tratar este tema yo comparto con la señora garrido de una forma integral

a la de las más jóvenes seguramente por educación por su propia realidad y por la historia que todos tenemos de la misma forma que defendemos la necesidad de tratar este asunto de una forma transversal por parte de la administración y que no quede circunscrito

ayer mismo podíamos leer en un medio de comunicación la aprobación por parte del gobierno vasco

para luchar contra la violencia machista y entiendo que todos compartimos este punto de vista

estábamos todos de acuerdo compartimos la necesidad de medidas específicas no se puede negar la contribución de los colectivos feministas en el logro de muchos de nuestros derechos actuales

por las políticas de prevención por la necesidad de formación y por supuesto la ley sobre violencias machistas llegará al parlamento y trabajaremos

lo único que diría que no es que no comparta sino que yo matizaría

creo que aunque todavía queda mucho por construir creo que se puede afirmar que se ha avanzado mucho desde esos

en el debate de esta iniciativa como digo creo que podemos ser optimistas y decir que la historia habla por sí mismo y de lo que había antes a lo que había ahora podemos decir que los avances ahí están y nos debiéramos felicitar por ello por tanto

de las iniciativas que tienen que ver con violencia machista no siempre somos capaces de poner en un mismo texto la firma de todos los grupos parlamentarios por tanto nada más y muchas gracias

el esfuerzo realizado y las medidas que se han adoptado lo que no impide reconocer que las mujeres jóvenes y mayores siguen sufriendo esta vulneración de derechos humanos y reconociendo también que las mujeres mayores necesitan también de acciones específicas la señora arana también ha hecho referencia

de igualdad señalando las necesidades

con el objetivo de desnaturalizar y concienciar sobre un fenómeno que todavía permanece en gran medida oculto a través entre otros de la creación de espacios de formación y debate así como a través de proyecto

fuente de aprendizaje para generaciones futuras ya lo decía el lehendakari y sí que me gustaría reseñar el programa

a un millar de profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia y es un compromiso fundamental

una perspectiva feminista tiene que sentar las bases

reparación y empoderamiento el punto tres también habla de mejorar la detección precoz y procesos de atención a mujeres mayores víctimas de violencias machistas importantísimo este punto ahora que se acerca el momento de elaborar el tercer acuerdo interinstitucional a fin de mejorar y reforzar todos los instrumentos necesarios para la atención de mujeres

al igual que recabar nueva información actualizada para noviembre de

que podría recabar más datos a fin de no replicar informes pasados y poder aportar

más informaciones también el punto cuatro

compartir experiencias reflexiones y demás con mujeres víctimas de violencia

de este tipo como ha podido ser la elaboración del documental volar muy exitosa una experiencia cruda pero

y pedagógica la verdad hablamos también

referencia al lehendakari porque la atención a esta realidad ha incorporado

y atender de forma integral a todas las víctimas hasta su completa recuperación incluidas desde luego las mujeres mayores y el último punto también seguir cumplimentado estudios e informes existentes muy importante para poder seguir diagnosticando y poder implementar medidas

en la línea de lo que estamos haciendo hoy que son detectar problemas específicos y

específicas creo que es un buen acuerdo creo que recoge propuestas concretas y muy necesarias y por todo ello nos felicitamos

quería hacer un apunte porque igual no se me ha entendido bien nosotras utilizábamos los datos de emakunde entre los años dos mil dos y dos mil diecisiete

hacemos referencia a ese dato pero evidentemente a quienes nos referimos son a las mujeres más mayores dentro de esa franja con lo cual no estamos pensando en mujeres de cincuenta simplemente utilizamos el dato de emakunde que es como ellas recogen los datos igual habría que hacer una aportación a emakunde para que

recojan otro tipo de sector de edad que parta igual a partir los

las expertas seguramente lo sabrán pero no estamos pensando en mujeres de cincuenta año sino más bien

muchas gracias señora presidenta señores consejeros señorías buenos días a todos me gustaría

en la sencilla moción que les propongo a ustedes debatir en la mañana de hoy es simplemente solicitar que el gobierno cumpla el compromiso que voluntariamente adquirió y el que tiene obligación legal de cumplir para

o traer a esta cámara un nuevo proyecto de ley que mejore la ley de aportaciones vigente la ley dos barra dos mil siete de veintitrés de marzo

que en realidad es el meollo de las finanzas de la comunidad autónoma vasca puesto que es la ley que tiene que definir

de distribución de los recursos financieros entre todas las instituciones vascas y al mismo tiempo tiene que determinar las aportaciones que hacen las diputaciones forales a los presupuestos

vasca es decir dónde va nuestro dinero cómo se distribuye y en qué se va a gastar lo decidirán posteriormente cada una de las instituciones en función de la aplicación de los distintos

mejorar es un compromiso que adquirió el gobierno en la persona del consejero de hacienda que es una lástima que hoy no nos pueda acompañar aunque bien sabe qué es lo que le voy a pedir en este debate

en diversas ocasiones un compromiso legal puesto que la ley que pedimos que se reforme

y que para el caso de que no hubiera una renovación a tiempo preveía una prórroga pues bien llevamos más tiempo de prórroga que de vigencia establecida de la propia ley

que hacía la previsión de dos mil siete no tiene nada que ver con la que tenemos en dos mil dieciocho con la que vamos a tener en dos mil diecinueve que es cuando nos gustaría a nosotros que esa ley entrara en vigor se han puesto distintas excusas a lo largo del tiempo para

una a una han ido todas decayendo y han terminado la última que nos pusieron es que la ley de instituciones locales de euskadi

que determinar si estaban bien o mal financiadas

institucionales en función de las competencias que las leyes y el estatuto les atribuían el informe ya está encima de la mesa el señor consejero hizo un juego extraño porque este informe lo trajeron año y medio más tarde de lo que tenían que hacer tenían un plazo de un año doce meses para elaborarlo

ese plazo y el consejero nos decía continuamente que era mucho mejor llegar a un buen acuerdo que no cumplir la ley es un juego

a mí desde luego no me gusta porque creo que es un argumento que no todos en este país que somos todos iguales no todos podemos utilizar puesto que los ciudadanos no pueden decir yo me voy a saltar el cumplimiento de los plazos legales

alegando simplemente que es que lo que quiere hacer es una buena liquidación en lugar de presentarla en tiempo porque entonces llegan las inspecciones correspondientes y le meten unos importantes recargos multas y sanciones

ningún cargo político ningún responsable público podría o debiera decir que se va a saltar los plazos legales simplemente porque lo que quiere no es una chapuza sino un buen acuerdo por lo tanto tenía una obligación legal que se está incumpliendo y por eso hoy les exhortamos señores miembros del gobierno a que traigan inmediatamente este proyecto de ley que pueden hacer exclusivamente ustedes porque el propio reglamento de la cámara no permite que sea una proposición

para dar cumplimiento a los incumplimientos del gobierno si ya tenemos una obligación legal y tenemos el compromiso de no solamente los representantes del gobierno porque no solamente ha sido

en ese tiempo no podemos dejar de lado y olvidar que el propio calendario legislativo que el gobierno aprobó

ya hace tiempo a principios de este dos mil dieciocho y el texto no ha llegado nunca también es cierto

qué es lo que nos decían los de barrio sesamo cuando hacían esas nociones básicas de arriba abajo cerca lejos proyecto de ley proposición de ley alguien dentro del gobierno tendría que haberlo mirado antes de traer ese calendario legislativo que nos han traído a la cámara para luego

en los plazos y entre ellos el de la ley de aportaciones que insisto exigimos que nos lo traigan antes de que finalice este ejercicio para que pueda entrar en vigor en dos mil dieciocho

si los informes están si la metodología está aprobada si hubo un consejo vasco de finanzas en febrero

sobre la metodología sobre ese informe y que iban a traer la ley este año qué es lo que está pasando alguien no nos está diciendo la verdad igual es que ese acuerdo no existe igual es que no es fácil llegar a ese acuerdo y eso que es curioso estamos viviendo un momento

va al alza se presupuesta una cantidad con la que todo el mundo está satisfecho se recauda todavía más hay más dinero para gastar pero aun así no se ponen ustedes de acuerdo

y no se ponen de acuerdo miembros del mismo partido porque podría ser complicado pensar por ejemplo en gipuzkoa gobernara un partido de un color

el territorio histórico de álava hubiera un gobierno diferente hombre concitar sensibilidades políticas proyectos políticos diferentes tiene que ser bastante complicado pero de hecho

entre diversos colores políticos se consiguió ese acuerdo y hoy que pertenecen todos al mismo partido no hay manera

se llegaban con mayor facilidad que lo que ocurre dentro del consejo vasco de finanzas porque no hay manera de que se pongan entre ellos de acuerdo en cómo se reparten el dinero a pesar de que todos están diciendo que hay que modificar esa ley lo ha dicho en diversas ocasiones

incluso los miembros del gobierno por no hablar señorías de la otra pata que nos falta en ese consejo vasco de finanzas que es eudel que también en su asamblea la mayoría de los miembros que representan a los ayuntamientos y entidades locales

tienen una mayoría monocolor del partido nacionalista vasco es decir todos los líderes de las instituciones del partido nacionalista vasco son incapaces

lo que se recauda en las distintas diputaciones forales de euskadi para qué pues simplemente para ver quien cumple

les decía al principio que la situación socio económica del dos mil siete a la de hoy es completamente diferente y es cierto hay instituciones que tienen que regirse y que tienen el dinero

en el dos mil siete toda la ley de dependencia toda la cartera de servicios sociales no estaba desarrollada en el dos mil siete y eso

y en menor medida los ayuntamientos de la comunidad autónoma vasca pero no cuentan con la financiación no está definido en la ley de aportaciones

el informe lile al que hacen tanta referencia desde el gobierno que era tan fundamental

es que los ayuntamientos cuentan con financiación suficiente para hacer frente a las competencias que tienen no se lo cree nadie

yo no he visto la rueda de prensa de eudel presentando ese informe y diciendo que están muy contentos con la financiación que tienen porque les llega para todo porque no es verdad porque los ayuntamientos las entidades locales las supramunicipales las cuadrillas por ejemplo o las inframunicipales o los concejos

para prestar los servicios que les exigen los ciudadanos servicios a los que las leyes les obligan por ejemplo estos de la cartera de servicios sociales pero ya no es un problema de distribución entre ayuntamientos diputaciones y gobierno vasco es que es un problema de aportación horizontal porque álava y gipuzkoa se quejan de que bizkaia recibe una

pero la ley está muy bien y por eso tiene un fondo para hacer los ajustes necesarios caray si las aportaciones son correctas según la ley para que necesitamos ese fondo

ese fondo sería absolutamente innecesario y dentro de la vigencia de la propia ley las distribuciones económicas serían las correctas

o una financiación excesiva sea el gobierno vasco porque miren en el dos mil diecisiete el gobierno vasco dejó una sin ejecuciones es decir

dónde lo iban a gastar lo había aprobado esta cámara tenían el dinero necesario porque no solamente tenían el dinero que estaba previsto en los presupuestos sino además tuvieron una sobre recaudación pues bueno les sobraron quinientos cincuenta y cinco de euros que decidieron no ejecutar porque no eran necesario para que se hagan una idea del importe o el volumen de esa cantidad les puedo decir que este año

de quinientos diecisiete millónes de euros es decir en dos mil diecisiete

no utilizar porque no hacía falta en un volumen superior

foral de álava pues entonces igual es que también hay que corregir los coeficientes verticales y de todo eso se tienen ustedes que poner de acuerdo sentarse

vasco de finanzas y realmente cumplir con la palabra dada ya dijeron en el dieciocho en febrero que tenían un acuerdo y que este año teníamos el proyecto de ley hoy los grupos que sustentan al gobierno han hecho una enmienda diciendo que lo que tiene que aprobar

por qué le exigen al gobierno que haga algo que ya ha dicho el gobierno que tiene hecho las declaraciones después de esa reunión de febrero

excepto los representantes de eudel que no las he encontrado en la hemeroteca decían que ya tenían un doble acuerdo para tener el informe en junio en mayo y para tener la metodología distribución aprobada en el consejo vasco de finanzas de este año para tener el proyecto de ley que se podría aprobar en esta cámara

de los grupos de la oposición lleguemos a un acuerdo y traigamos un proyecto de ley para suplir las incompetencias del gobierno que ha sido incapaz en todo este tiempo

exigimos y exhortamos mediante esta sencillísima moción para que pedimos su apoyo

el ejercicio dos mil dieciocho el proyecto de ley de renovación de la ley de aportaciones esté en la cámara porque si han sido incapaces

de encerrar a todos esos líderes en un batzoki durante dos tres cuatro cinco días

qué va a ocurrir a partir de ahora tenemos unas elecciones locales y forales a la vuelta de la esquina seguramente las mayorías que les den los ciudadanos o que nos den los ciudadanos exijan que haya cambios de color en los distintos gobiernos de las diferentes instituciones en euskadi

en el gobierno vasco todavía no porque las elecciones autonómicas no nos van a llegar en mayo pero si ustedes

después de mayo con los cambios en todas las instituciones y fíjense otra cosa estamos entrando en unos momentos ese término que tanto le gusta

teníamos dinero más que suficiente y la recaudación iba muy por encima un seis un ocho un diez por ciento por encima de lo previsto

determinaba con los límites presupuestarios para cada institución qué va a ocurrir cuando las cosas vayan a mal y cuando haya menos dinero porque si estamos desacelerando nuestra economía la recaudación va a ser menor por lo tanto

a una menor cantidad de dinero para cada institución es ese el

antes de que las cosas se pongan más difíciles yo creo que lo lógico y lo normal es que ustedes hoy apoyen esta sencilla moción y exijamos todos al gobierno y antes de que finalice el año el proyecto este encima de la mesa de este parlamento tal y como se comprometió

al traerlo dentro del calendario legislativo que debiera haber cumplido este año muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

egun on guztioi vamos a debatir en este punto del orden del día en esta ocasión una moción anteriormente en esta cámara fue una proposición no de ley presentada también por el grupo popular relativa al proyecto de ley de aportaciones del país vasco pocas novedades en la argumentación del proponente desde aquel tiempo hasta ahora y eso que ha transcurrido un año y pico y la verdad es que tiempo le hubiera dado para traer cuestiones de sustancia o de contenido con respecto a cuáles son esas modificaciones que a usted le parecen tan sencilla de llegar con respecto a la modificación de los coeficientes verticales los horizontales

en estos maravillosos quince minutos que nos ha dado de intervención con respecto a la moción

a los proponentes tal y como ya hicimos desde el grupo socialista el año pasado

le digo del debate que ustedes instaron y que en aquel momento llevó el señor anton damborenea que

en un artículo el número veintidós de la ley veintisiete barra mil novecientos ochenta y tres de veinticinco de noviembre de relaciones entre las instituciones comunes de la comunidad autónoma lo que usted conoce con esto que le gusta abreviar por la ley de territorios históricos que establece que será

o no el consejo vasco de finanzas públicas quien aprobará la metodología de distribución de recursos y la determinación de las aportaciones de cada territorio histórico a los gastos presupuestarios de la comunidad autónoma y continúa este artículo veintidós que le estoy mencionando

eleve a esta cámara el correspondiente proyecto de ley que incorporará la metodología acordada en este consejo vasco de finanzas por tanto difícilmente va a poder el gobierno presentar ese anteproyecto de ley que usted le insta desde esta cámara si previamente el consejo vasco de finanzas donde están representadas cuatro instituciones no llegan a un acuerdo por muchas premuras que su grupo parlamentario quiera imponer y urgir desde esta cámara le recuerdo que esta es una norma que está en prórroga desde el año dos mil once

esa insistencia que les estoy escuchando ya en el pleno de control cuando se dirigió usted al consejero de hacienda y la que ha hecho desde esta tribuna con respecto a que cuando un partido

le voy a recordar que los partidos políticos gobiernan para el bien de los ciudadanos y para conseguir

partidistas yo no sé si eso a usted le queda claro que las instituciones no se patrimonializan desde los partidos sino que se defienden los intereses ciudadanos en cuanto a que tienen que tener lo que se le dijo financiación suficiente para cumplir con las competencias y que se tiene que hacer también lógicamente desde la solidaridad de aportaciones entre todas las instituciones por tanto serán las instituciones representadas allí no los partidos políticos las instituciones representadas allí quienes tengan que llegar primero a un acuerdo

sobre la misma para ver si apoyamos o no apoyamos la propuesta presentada

yo no sé qué periódicos lee usted yo también reviso antes de venir a las intervenciones de esta cámara un poco la hemeroteca

todas las noticias que aparecen es que una vez que se tendría el informe

algunas recomendaciones con respecto a que se tiene que modificar o incorporar al cálculo de la metodología determinadas cuestiones sí aparece en esta norma bien es cierto

tener datos técnicos puesto que con el discurso que nos ha hecho usted

subiendo y bajando los décimales vamos para algún territorio concreto

ajustar números y no de tener datos con respecto a cómo se tiene que modificar creo que incluso hace un año se nos dijo que la primera ley de aportaciones no había tenido absolutamente ninguna base técnica sino que se había puesto

más o menos fue así el argumento que utilizaron cualquier intento de promover aquí otro acuerdo por parte del parlamento no va a servir para nada puesto que aunque el gobierno quiera darle cumplimiento su voluntad queda condicionada a que se apruebe previamente por el consejo vasco de finanzas sí es cierto y se lo dijimos en su momento que la ley de aportaciones para nosotros es también una ley esencial para la implementación fundamentalmente

institucionales y eso es la ley que determina qué recursos tiene cada uno de ellos para financiar las competencias que tienen atribuidas es una ley que tiene que definir la financiación de un modelo de país

los niveles institucionales para poder prestar todos los servicios públicos desde y no se olvide la solidaridad de aportaciones de las tres haciendas forales

no partidario en el que hay que conjugar el equilibrio entre la suficiencia financiera y las aspiraciones que cada administración tiene que no partido político

inste al consejo vasco de finanzas y a las cuatro instituciones que están allí representadas para que cumplan con el compromiso de cerrar ese acuerdo antes de que finalice el año dos mil dieciocho porque eso permitirá que en el siguiente ejercicio dos mil diecinueve esta cámara pueda

lo de predicar que dar trigo le voy a recordar que su grupo parlamentario tiene una proposición de ley presentada hace más de un año en esta cámara

y que a fecha de hoy no sabemos muy bien por qué sí ni por qué no
no la han querido poner en marcha eskerrik asko

lotutako gogoeta bat baina esan duzu dado que no se nos permite a los grupos de la oposición de forma

una alternativa a este texto legal vamos a presentar esta moción para que entre bildu podemos y el partido popular

ustedes y su grupo parlamentario que se niega a dar el apoyo al gobierno vasco para poder aprobar una ley con carácter anual como los presupuestos haya mostrado su disposición

a presentar con bildu aquello que usted ha calificado como una de las leyes más importantes para la financiación de las instituciones vascas una ley

y cuál es la verdadera voluntad con esto de hecho hoy vamos a ver cómo probablemente se apruebe su moción sin una enmienda transaccional no se aprueba porque probablemente lo que no quiere es visualizar lo que en el fondo subyace

para poder acordar y aprobar algo con bildu sin embargo al partido nacionalista vasco a nuestro grupo parlamentario al gobierno usted pretende poner dificultades en ese sentido aipatu izan duzu baita

ley lleva más tiempo llevamos más tiempo en prórroga que lo que la vigencia de la ley propiamente dicha tendría que ser y se refería usted y unía con que el consejero dijo que es mejor llegar a un buen acuerdo que cumplir la ley

perfectamente prevista precisamente en la ley en su disposición

bueno defender lo indefendible parece que se lleva

que sustentan al gobierno la verdad es que el debate sobre la ley de aportaciones cada vez se parece más al día de la marmota el gobierno sale de la madriguera pero meses después vuelve a entrar en ella eta ez dakit gobernu honi

lanean ari gara baina etor zaitez bihar bueltan y es que parece que siempre que preguntamos al respecto al señor azpiazu está a punto de cerrar la ventanilla

institucional o de responsabilidad porque en este asunto

lealtad institucional y responsabilidad porque tener prorrogada una ley durante siete años no es lealtad a la institución y sobre todo es una gran irresponsabilidad por parte de los distintos gobiernos qué casualidad que actualmente están sustentados por los mismos partidos políticos por el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi y ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que el ventilador de la propaganda

así no se resuelven los problemas de la mayoría social y leíamos en febrero como decía el señor ruiz de arbulo tras la reunión del consejo vasco de finanzas

a cerrar en unos meses un acuerdo sobre la nueva ley de aportaciones para poder presentarla en el parlamento vasco antes de fin de año y visto lo visto otro sapo que tragar por parte de un gobierno débil que por enésima vez tendrá que dar explicaciones sobre este tema baina gaur gainera

vengan ustedes mañana poniéndose de lado por enésima vez a la hora de afrontar la lealtad institucional con responsabilidad beraz

ekarpen lege berritu bat izatea zeinek azken urteotan egon diren aldaketak barne hartzen dituen y por eso es necesario una ley de aportaciones que permita que los municipios

actualmente cada territorio histórico destina a sus municipios un porcentaje diferente de los recursos disponibles

que en ermua a dos kilómetros de distancia se recibe más dinero por el hecho de pertenecer a bizkaia miren de media entre los años dos mil once y dos mil diecisiete años

los ayuntamientos de gipuzkoa han recibido quinientos veinte euros per cápita menos

por la irresponsabilidad de mantener prorrogada la ley de aportaciones desde el año dos mil once baina kontuz

determine un porcentaje mínimo idéntico para los tres territorios históricos y que incluya criterios homogéneos para el reparto de los recursos entre las entidades locales y en este sentido desde elkarrekin podemos entendemos que la revisión de la ley de aportaciones debería basarse en dos premisas que además van en línea con las conclusiones y recomendaciones del informe del análisis general de las competencias propias y de la financiación

en primer lugar está claro que los coeficientes horizontales necesitan una revisión así como también lo necesita el fondo general de ajuste

se cumpla efectivamente porque no se puede tolerar que los territorios no tengan recursos suficientes para afrontar sus políticas y básicamente porque ello tiene como consecuencia

las mayores perjudicadas de una gestión política por decirlo con palabras suaves algo más que mejorable y en segundo lugar los coeficientes verticales también

de algunos derechos sociales y el despliegue de la cartera de servicios sociales que representan nuevos retos para diputaciones y ayuntamientos como anteriormente decía el señor ruiz de arbulo y es por eso que debido a estas nuevas obligaciones los coeficientes verticales debieran ser actualizados

a los servicios sociales pueda ser ejercido por la ciudadanía vasca a la vez que toda administración pueda prestarlos siempre y cuando su ciudadanía

y por eso es necesario que las entidades locales cuenten con un coeficiente de participación suficiente

entendemos que es un fiel reflejo del proyecto de país que queremos y desde elkarrekin podemos en ese sentido apostamos sin duda alguna por un país donde el municipalismo

no queremos más despotismo ilustrado y por ello reclamamos una mayor independencia y capacidad financiera de las entidades locales que nos permita ahondar en políticas municipalistas de verdad una mayor independencia y capacidad financiera para que las entidades locales

el último escalón inferior a la administración autonómica o a la provincial sino que sean espacios reales de autogobierno porque entendemos que hay que reivindicar la autonomía administrativa local y reclamar la gestión de lo político económico y social en términos municipales

de dar a las entidades locales como administración más cercana a la ciudadanía el lugar que se merecen y para terminar sinceramente creo

tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien pero no vale dilatar sine die la apertura del melón de la ley de aportaciones

no se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy y el señor azpiazu precisamente lo que está haciendo es evadir su responsabilidad

epe baten epe betetze formala baino y así reclamando el informe que debía de servir de base para elaborar la nueva ley de aportaciones

de retraso llegamos al verano de este año dos mil dieciocho en el que conocimos

y después más ya en el otoño estuvimos en la presentación por parte del gobierno del informe en este parlamento es de sobra conocido que para euskal herria bildu el informe presentado no responde a lo acordado

y lo dijimos en la comparecencia del gobierno dijimos que era necesario aclarar el marco de las competencias propias y la financiación de los distintos niveles institucionales para asegurar

que ese y no otro era el fin acordado del informe porque entendemos que es necesario conocer bien la situación actual de nuestras instituciones

lo que sea necesario lo que sea necesario de cara a asegurar un nivel de financiación suficiente y acorde con las competencias de cada nivel porque tras la aprobación de la ley de las instituciones locales es todavía

correcta y justa de los recursos que responda a las necesidades de las instituciones y a la realidad de sus competencias porque es por todos conocido que los diferentes niveles institucionales ya lo vienen reclamando desde hace mucho tiempo hori argi eta garbi

a la señora pinedo y al señor bollain que en nombre del grupo

sencilla moción que hemos presentado hoy aquí que efectivamente pues no tiene muchas novedades señora castelo los argumentos son los mismos es que cuando uno tiene la razón y cuando lo que dice es verdad no es necesaria inventar argumentos distintos u ocurrencias nuevas

y saca argumentos para cada debate pero yo prefiero ser mucho más aburrido mucho más triste y mucho más regular venimos insistiendo todos los grupos de la oposición y hoy va a salir aprobado por mayoría fíjese usted grupos tan distintos como elkarrekin podemos eh bildu y el partido popular

su palabra nada más y usted comprendo que tiene un papelón

a defender una moción en nombre de los grupos que sustentan al gobierno y yo miro remiro y no dejo de mirar las fotos de las distintas reuniones del consejo vasco de finanzas y ahí no veo ningún representante del partido socialista son todos del partido nacionalista vasco y yo en ningún momento he dicho que la culpa sea del gobierno de los grupos del gobierno de los partidos de gobierno que no

y tener que defender algo que ni les va ni les viene pero que les hace responsables de una irregularidad

yo no he dicho que sea ilegal no yo he dicho que el señor azpiazu vino aquí y alegremente dijo me salto el plazo que la ley de instituciones locales de euskadi impone de un año porque es mejor saltarse el plazo para conseguir un acuerdo bueno vale eso es cometer

exige otra serie de cumplimientos que el consejo vasco de finanzas no ha hecho como por ejemplo fijar porque dice que deberá no que podrá que deberá fijar y ya está en vigor esa ley un porcentaje mínimo

a las entidades locales de euskadi y no lo ha hecho sigue siendo una recomendación

en el debate de esa ley el señor erkoreka recordará perfectamente que fue un punto de mucha discusión entre los diferentes

luego sí están cometiendo ilegalidades además de

es que la culpa la tiene madrid porque lo del cupo no está aprobado oiga que ya está

es que la culpa es de los expertos que no han hecho el informe caray pero sin son ustedes los que tienen que sentarse a hacer el informe

que en este caso ustedes siguen con la matraca de siempre de echar la culpa a otro pero es que ese otro es el partido nacionalista vasco son exactamente

y son ustedes los que están incumpliendo porque son ustedes los que lideran las instituciones que dentro del consejo vasco de finanzas tienen que traer aquí claro yo le exhorto al gobierno vasco hombre porque lo lidera el consejo vasco de finanzas qué quiere que se lo pida al olentzero

a quién se lo vamos a pedir si no se lo podría pedir al partido nacionalista vasco sí pero me dirían que no que legalmente no está previsto que sea el pnv el que tiene que traer ese acuerdo sino que son

la obligación de traer ese proyecto aquí obligación legal y además

si no lo iban a cumplir si no tenían intención de cumplirlo por qué han dicho que lo van a hacer

al señor gatzagaetxebarria al señor erkoreka en esta legislatura al señor azpiazu

que es otra de las mentirijillas de voy a proponer todas estas leyes para este año

ustedes lo propusieron y ustedes tienen que cumplirlo y hoy la cámara les pide que lo cumplan y sabe cuál es su problema parte de un acuerdo o una bronca interna dentro de su partido

el problema es que no tienen un modelo porque si ustedes tuvieran un modelo concreto de país un modelo de distribución de poder un modelo de distribución de competencias un modelo de distribución de las finanzas públicas

una obsesión por copar el poder y con eso no salimos adelante y con eso incumplen no solamente las leyes sino la palabra dada

incumpla la palabra dada me parece bastante vergonzoso señora gorospe eskerrik asko

gracias señora presidenta señor arbulo tiene usted una preocupación

a usted no le gustará lo que yo le digo o no le gustará que yo tenga más argumentos que usted

en esta intervención como no lo hizo el señor damborenea el anterior año absolutamente ningún argumento para esa modificación de la ley de aportaciones bien es cierto que les viene a ustedes muy bien que desde febrero del dos mil diecisiete hasta octubre de dos mil dieciocho la ley de aportaciones se les quedo por ahí perdida ahora la retoman hombre yo no dudaba

ni de eh bildu que en este caso aun a pesar de los argumentos dados por la portavoz de eh bildu que según su argumentación mantenida fundamentalmente también con lo que había comentado usted en el anterior debate que habíamos tenido en esta cámara en febrero del año dos mil diecisiete

de que el consejo vasco de finanzas tiene que llevar ese acuerdo y que por tanto instar

le obligue el gobierno a presentar un anteproyecto de ley que no se puede cumplir puesto que si el consejo vasco de finanzas no llega a ese acuerdo de forma previa y su compromiso es hacerlo antes de que finalice el año

siguiendo su argumentación me ha parecido incongruente que vayan a apoyar la enmienda original la propuesta original que creo que es lo que les he entendido pero bien es cierto que en parte de lo que se decía por ustedes en aquel momento

compartimos parte de ellos hay que conocer bien las cuestiones de cómo ha funcionado esta ley de aportaciones en una ley que está en prórroga prórroga legal

cuando pueda ser sustituida por otra tendremos una nueva ley mientras tanto funcionamos con la que conocemos

para qué para corregir aquello que sea necesario para asegurar fundamentalmente un objetivo exclusivamente que es la financiación adecuada y justa

de la cámara la necesidad de una nueva ley de aportaciones y es verdad que nosotros creemos que esta ley tiene que estar basada también en una perspectiva de

de los intereses partidistas o de las visiones parciales de cada una de las instituciones por tanto hasta ahí todos de acuerdo

podamos aprobar en este parlamento que el gobierno vasco presente un anteproyecto de ley antes del día treinta y uno de diciembre porque saben ustedes que eso

votación que han perdido los grupos que sustentan al gobierno en este día de pleno ordinario pero saben ustedes que no tendrá ninguna virtualidad por tanto eso de que el señor arbulo me decía que a los socialistas ni nos va ni nos viene pues no va y nos viene no es que nos vaya o nos venga debate concretamente con respecto a su moción porque ya le digo que de contenido concreto hemos hablado poco pero sí que nos va y nos va mucho que haya una nueva ley de aportaciones en la que en el fondo se recoja una buena financiación para los tres niveles instituciones alejado

le parecen una opción perfecta para poder llegar a un acuerdo nosotros lo que le pedimos en nuestra

es que el consejo vasco de finanzas sí cumpla con ese

antes de que acabe este año dos mil dieciocho podamos tener una metodología aprobada la última reflexión

en su momento cuando se discutió aquí hace un año y medio el partido

de elkarrekin podemos el portavoz

en aquel momento su discurso era más de necesitamos una reforma fiscal

hoy estamos creo recordar que a seis meses de unas elecciones municipales bueno hoy hemos tenido una visión de defensa de la ley de aportaciones desde el municipalismo por qué será pues no lo

esan duzuna enmienda que no dice nada una enmienda eta nik esan behar dautsudana que lo que nuestra enmienda dice es que respetemos por unanimidad han decidido en un órgano interinstitucional donde están representantes de todos los niveles institucionales de euskadi elegidos en el ejercicio de la democracia representativa por tanto

akordio ezberdinak eta azkenerako lo de no tienen modelo ustedes no tienen modelo de país no tienen modelo de financiación mire yo cuando quiera usted mire nuestro modelo se llama modelo vasco de desarrollo humano sostenible y cuando quiera usted con dos minutos tres segundos no me da para poder hacer un análisis comparado

de indicadores distintos tanto de la situación económico financiera de los resultados que el modelo que se está llevando a cabo desde el gobierno vasco está dando cuál es la situación económico financiera de euskadi

de otros muchos lugares donde ustedes gobiernan cuando quiera hacemos un análisis comparado cuando quiera hacemos también un análisis comparado de cuál es el nivel de bienestar de la sociedad vasca y cuál es el nivel de bienestar con indicadores objetivos usted puede elegir los indicadores que quiera y

de aquellos lugares donde ustedes están gobernando también le reto si quiere que podamos hacer un análisis comparado de cuál es el nivel de desarrollo económico en euskadi y cuál en otros lugares cómo puede decir que no tenemos modelos

resultados que ha tenido buenos resultados en su situación económica en la financiera

en el nivel de satisfacción también que tiene puntos de mejora y que para ello

decía la señora castelo que anteriormente

a ese respecto nosotros hablábamos de la reforma fiscal lógicamente solo hay que seguir las comparecencias que he hecho y la posición de nuestro grupo respecto a los presupuestos

la reforma fiscal aún sigue siendo necesaria para nosotros y la vez anterior ya lo dijimos no solo se trata cuando hablamos de la ley de aportaciones para elkarrekin podemos

sino también del tamaño de pastel y nosotros entendemos que el pastel debe ser bastante más grande de lo que es ahora simplemente por hacer un cálculo sencillo si igualásemos la presión fiscal de euskadi a la media de la presión fiscal europea al año ingresaríamos

adicionales entonces sin duda esto es un punto interesante para nosotros lo que pasa es que no creía que hoy era el día para desviar una moción con un

muy sencillo y el cual tenía una dirección muy clara que era que el gobierno

de ley de aportaciones antes de que finalizase el año y si tanto le preocupa a usted

y por qué defiende los intereses del partido nacionalista vasco en los ayuntamientos

que decía la señora gorospe que tenían modelos

de país yo ya le he dicho desde un principio en mi primera intervención que desde elkarrekin podemos apostamos por un país donde el municipalismo lejos

este gobierno que no se entienda como lo hace este gobierno un municipalismo que dé a los municipios y a las entidades locales el puesto que realmente merecen como

sabes qué es lo que pasa que da la sensación por lo menos que el partido nacionalista vasco no renueva la ley de aportaciones para poder

municipios que no son de su cuerda política vamos para tejer una red

en base a las ayudas que se otorgan a los ayuntamientos y así es como ustedes así es como el partido nacionalista vasco entiende la política municipalista

así la entienden ustedes dar a los suyos y poner la soga al cuello de los que no son suyos eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna

de la propuesta del partido popular luego esos argumentos de con quién acuerda uno no acuerda otro no seré yo

no he acordado con el partido popular que si hay que acordar pues no se me van a caer a mí los anillos porque creo que estamos en política

las cosas que consideramos justas adelante pero bueno que eso

la señora castelo entraba en mi argumentación y evidentemente que he utilizado argumentos similares

en el anterior debate y

que veía cierta incongruencia entre mi argumentación y el voto de mi grupo mire

no hay ninguna incongruencia y por una cuestión muy sencilla yo no he dicho y además es que en mi propia intervención lo he dicho muy claro que sé lo que va a pasar

como mucho a final del ejercicio tendremos en el consejo vasco de finanzas la metodología pero he dicho como mucho y por qué he dicho como mucho porque no es la primera vez que el consejo vasco de finanzas se compromete a algo en relación a la ley de aportaciones

y no lo cumple y no me refiero a esta legislatura incluso en la legislatura anterior también hubo

y por una cosa o por otra y lo he dicho en mi intervención que me da igual por cuál

que estamos en el dos mil dieciocho y la ley de aportaciones no está encima de la mesa y sabe qué pasa que es que yo pertenezco a un grupo de la oposición y por lo tanto mi función es hacer control al gobierno y he dicho en mi intervención que creo que el gobierno tiene que cumplir su propio

y sé perfectamente que esta ley tiene detrás claro que lo sé claro que lo sé pero el gobierno se comprometió a traer esta ley en un periodo concreto

en la que usted no estaba en esta cámara y yo recuerdo muchas conversaciones con el señor gatzagaetxebarria en relación

y podía entender más menos o a la mitad sobre por qué no llegaba esta ley pero la realidad es que esta ley no está encima de la mesa y creemos que tenemos que hacerle

de verdad que sigamos hablando de la financiación y hoy aquí en algún momento hasta a algunos se le ha olvidado que los ayuntamientos

se le ha olvidado porque no se quiere recordar y evidentemente

un día sí y otro también están reclamando mayor financiación y no vale ir con el cuento de que tienen camino subiendo los impuestos locales porque eso se dice en fútbol

lamentablemente se viene a decir que todo está bien y si todo esta tan bien una no acaba

por qué no se llega a un acuerdo y le aseguro que no será solo por las administraciones locales miren ustedes en las diputaciones a ver lo que pasa eskerrik asko

duintasun demokratikoa eta oinarrizko eskubideak por esa razón hemos traído una proposición no de ley sobre el valle de cuelgamuros

de los caídos la razón que anima nuestra iniciativa es de dignidad democrática y de compromiso en la defensa de los valores y los derechos humanos básicamente estamos hablando de una fosa común de enormes proporciones en la que yacen los restos de miles de personas asesinadas o fallecidas por motivos políticos

además contra la voluntad de sus familiares pensamos que hay pocas cosas

pero esta conculcación evidente y palmaria del más elemental sentido humanitario no es algo que ocurrió y ya está por eso hoy

busca que la verdad la justicia y la reparación de tanto daño sean por fin atendidos esta iniciativa busca dignificar la situación de miles de personas asesinadas

los valores democráticos o acaso es posible que en una democracia perduren mausoleos de dictadores genocidas

a un dictador y a las ideas totalitarias que estos impusieron a través de una represión y una persecución extremadamente violenta es del todo inaceptable

una dictadura que acabó con una república democrática y cercenó durante cuarenta años derechos civiles políticos de orientación sexual y las más elementales libertades fundamentales por eso nosotras y nosotros pensamos que es una excelente noticia que esta iniciativa que traemos

mayoría de este parlamento la nota discordante parece ser que la pondrá el partido popular que ayer tuvo una actitud

solo en una cuestión que como decía para nosotras es de dignidad democrática y de derechos fundamentales porque no estamos hablando hoy de las batallas

estamos hablando de una flagrante vulneración de derechos humanos en el presente

aquí y ahora hemen eta orain esto no es sobre el ayer es sobre nuestro hoy y sobre todo a la vista del auge de las extremas derechas de nuestro mañana

en el que no quepa ningún margen a la extrema derecha ni un milímetro de cesión ante quienes quieren volver a nuestro pasado más oscuro ni un milímetro ante partidos fascistas en auge en una europa rota por el neoliberalismo y la austeridad el valle de los caídos es hoy en día un lugar con toda la parafernalia propia de la dictadura nacional católica

es un lugar de culto del partido de corte fascista que apoyo a los golpistas y sobre todo es un centro de humillación a las víctimas de un genocidio

hoy en el año dos mil dieciocho los restos de miles de víctimas de la dictadura

contra la voluntad de sus familias la de sus amigos la de sus camaradas

clavada a modo de espada para recordarnos que siguen presos para recordarnos

que los fascistas impusieron con sangre se castiga se reprime se paga con el más alto precio

ya que murió el dictador y es por lo tanto en opinión de nuestro grupo responsabilidad nuestra de la sociedad actual y de las instituciones del presente permitir o no

como el valle de los caídos que es utilizada para hacer apología de la dictadura que sufrimos en este país miren escribía hace unos pocos días

que la existencia del valle de los caídos no era una herencia de la dictadura sino una responsabilidad de la democracia creo que no le faltaba razón

es porque se está permitiendo que así sea y eso se tiene que acabar hoy lo que toca es pasar de la indignación a la proposición

indignarnos ante la normal desfachatez con la que se enaltece una cruel dictadura y pasar a la proposición

ese es el objetivo de esta iniciativa y otras que estamos llevando en diferentes instituciones que esto no sea lo normal cada veinte de noviembre

es que acaso las instituciones y las autoridades públicas no tenemos la responsabilidad y el deber moral y político de evitar el enaltecimiento del franquismo la realidad hoy es sangrante a este respecto la misma normalidad con la que se ensalzan esos valores antidemocráticos

o los privilegios de la iglesia entre otras cuestiones por eso hemos propuesto en el congreso y hoy aquí también

para que ese lugar se resignifique y se convierta en un lugar público donde explicar la historia del golpe de estado y la larga dictadura que sufrimos durante cuarenta años

justo la antítesis de lo que significa actualmente el valle de los caídos

de los valores del franquismo de la dictadura y del nacionalcatolicismo y esto no se puede hacer manteniendo la simbología de la dictadura

no se puede hacer si se deja a cargo del recinto a una congregación religiosa elegida por el propio dictador para ello por cierto unos jetas que viven

hay que atender los derechos más elementales de las familias de las víctimas del franquismo el derecho a conocer la verdad el derecho a identificar los restos de sus madres de sus abuelos de sus hermanas

y hacerlo y esto es muy importante garantizando la tutela judicial de los procedimientos de exhumación

y tienen por lo tanto derecho a la justicia justicia

hoy reinante no se puede seguir haciendo oídos sordos en ese sentido a las naciones unidas y otros organismos internacionales que han insistido en la necesidad

de que se esclarezcan responsabilidades en relación a los crímenes del franquismo se tienen que llevar a cabo las investigaciones judiciales oportunas y se tienen que juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país

que según el derecho internacional ni prescriben ni pueden ser amnistiados crímenes que por lo tanto

sin justicia no hay democracia sin justicia no habrá democracia y finalmente

ni más ni menos la parte que le corresponde para garantizar que las victimas de origen vasco que se encuentran en el valle puedan tener verdad justicia memoria y reparación y para garantizar que sus restos puedan ser exhumados y ser depositados de acuerdo con familiares y también de acuerdo con sus organizaciones en el caso

donde corresponde para darles el reconocimiento que se merecen reconocimiento que merecen como víctimas pero también

a nuestro grupo no se nos puede olvidar que la mayoría de esas víctimas lo son por defender la democracia

que tanto se está utilizando estos días no se puede ser demócrata sin ser antifascista eskerrik asko

hobi komun handiena da porque no es solamente un símbolo del franquismo empleado por fascistas para su enaltecimiento como estamos viendo estos días es también el símbolo del sufrimiento de miles de víctimas del franquismo del fascismo llevadas allí clandestinamente para

otra vez sin honor sin nombre a espaldas de los suyos desposeídas de su identidad y por ello de su dignidad entre ellas

son ciudadanos de euskal herria nafarroa ya inició su camino para recuperarlas al menos consiguieron devolver a sus pueblos a ciento treinta y tres de aquellos cuerpos

para rellenar los columbarios del valle de los caídos era mil novecientos ochenta y llamaron operación retorno

navarros tomando la iniciativa y reclamando en madrid los cuerpos hoy en día

han dado más pasos disponen de una ley de memoria histórica que regulariza esas y otras iniciativas les da amparo legal convierte las políticas públicas de memoria

urrats bat ematen dugu baina tamalez ezin dugu guztiz babestu por supuesto estamos de acuerdo en que se lleve a cabo una investigación pública exhaustiva para la identificación de estas personas por supuesto que queremos

para exhumar y repatriar a euskal herria los restos mortales de republicanos milicianos gudaris todos los ciudadanos vascos que se arrancaron de su tierra

en ubicaciones situadas cerca de los suyos las ya existentes o que se tengan que construir pero con la participación de sus familiares de sus organizaciones para que estas víctimas tengan todo su reconocimiento y reparación pero como decía desafortunadamente nos hemos encontrado con una dificultad

que esta labor radique en gogora como se ha introducido en la transacción no con las atribuciones que actualmente tiene no con las formas de actuar y con las actitudes que mantiene porque las familias nos han expresado la absoluta falta de sensibilidad que ha mostrado gogora para con sus reivindicaciones

con la nula disposición que han encontrado para acogerles y para acompañarles porque no han sentido ninguna empatía por parte de gogora

que iniciaron ya hace demasiado tiempo y que todavía se ven obligados a desarrollar en solitario tal vez y aquí está el quid de la cuestión

funciona a golpe de voluntarismo porque reacciona cuándo cómo y sobre lo que quiere y lo hace porque no disponemos de una ley

redactada por este parlamento que envíe un mandato claro directo a gogora de lo que debe o lo que no debe hacer porque debe existir una obligación imperativa de actuar que lo haga por mandato legal no dependiendo de la voluntad o tal vez el capricho

responsables precisamos de una ley de memoria histórica que dé cobijo a las víctimas del franquismo y las iguale a aquellas que están más reconocidas y reparadas como dijo un familiar de víctimas del franquismo

asociación de familiares por la exhumación de los republicamos del valle

eguerdi on buenos días bueno ya mediodía a todos y a todas

víctimas y asociaciones que puedan estar viendo este

autodenominó el valle de los caídos porque nada es casual ni involuntario en este valle el dictador

de su cruzada y de su españa nacional católica fue su decisión y fue su obsesión decía el decreto de mil novecientos cuarenta la dimisión de la cruzada no puede quedar perpetuada por los sencillos monumentos

es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos para que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los héroes y a los mártires de la cruzada así lo proclamó y es pues el monumento tal y como lo constituyeron de la victoria del nacional catolicismo se han dicho los números de las personas que desgraciadamente han sido víctimas tanto ellas las que sin ningún tipo

fueron asesinadas por segunda vez metiéndolas de relleno ante la falta de voluntarios de los caídos del bando nacional sin permiso de sus familiares utilizándolos como elemento de construcción a modo de relleno

panteón y las volvieron a matar de esa forma porque exhumaron cadáveres del bando republicano personas fusiladas o muertas en el frente a las que después de asesinadas

en segunda ocasión llevándolas a compartir esa tumba de relleno con los caídos por dios y por españa y con el general

el conjunto construido y denominado valle de los caídos constituye uno de los relatos franquistas de la segundo y su dictadura uno de los más paradigmáticos pero no cualquier relato

y como recursos humanos durante más de veinte años a los presos políticos

cautivos de guerra y republicanos que trabajaron en condiciones extremas de viento frío hambre humillación y explotación muchos quedaron allí

la gracia de ser considerados pecadores a los que les restaron prisión por redimir sus afrentas al poderoso con trabajo y sacrificio es el relato

un relato franquista de una historia solo franquista con un título fascista el valle de los caídos revindicamos por eso desde el grupo socialista que hay que poner fin a todo ese relato y a todo ese a esa perversión que nos ha acompañado durante mucho tiempo lo hemos dicho y se ha señalado cuales son las decisiones que se adoptan en la enmienda transaccional en primer lugar yo quiero manifestar el agradecimiento a los grupos proponentes porque es un debate bien traído

vasco porque finalmente ahonda en las pretensiones de memoria histórica que nunca han abandonado a las instituciones a las organizaciones memorialistas y a las organizaciones históricas que sufrieron a franco y al franquismo y ya se están tomando medidas hace escasamente

se acordó por el congreso de los diputados con la inmensa mayoría de las fuerzas políticas sacar de allí a franco porque ni hitler ni mussolini están enterrados con honores y tampoco lo seguirá estando franco

ni en la almudena no quiero pasar por alto tampoco el escenario

de tratamiento al valle de los caídos de que sea un espacio de reconciliación no es un espacio de reconciliación y jamás será un espacio de reconciliación porque permítanme una humilde opinión no puede ser símbolo de reconciliación lo que es ejemplo y modelo de represión

a sus víctimas eso lo pretendió el propio dictador franco antes de la inauguración pero él mismo se traicionó en el discurso de la misma en la que decía

podamos descansar la anti españa fue vencida pero no está muerta hay que estar atenta periódicamente la volveremos a ver levantar la cabeza y habrá que bajarla

que esa sea la reconciliación una reconciliación que nos humilla es cierto todo lo que han dicho

de enaltecimiento franquista que se ha mantenido como en formol

en el crucero del templo debajo de la inmensa cúpula con más de cinco millónes de teselas en las que se narra la historia de una españa solo una españa la franquista hoy igual que ayer pero debo de decir que espero que no por mucho tiempo ya

permanecen sin poder identificar exhumar y trasladar a los lugares de origen a sus familiares es hora ya se ha dicho antes por parte del señor hernández es hora de acabar

lo que él significa tiene que ser ahora y ya y tiene que ser sin mirar atrás vamos a identificar los restos mortales de las víctimas del

conforme a la voluntad de sus familiares ahora ya también tocaría la resignificación de ese monstruo pero

yo creo que pocas al margen de honrar a las víctimas que allí están eliminar todos los elementos franquistas y fascistas

quitarlo de los lugares de peregrinación para honrar

y atender a las víctimas poco más se puede hacer con el valle de los caídos a lo mejor es hora de dejarlo allí para siempre

porque veo dificultades para que en algún momento como se ha propuesto eso sea un monumento a la concordia y mucho menos

a todas las víctimas cuando todas las víctimas no fueron tratadas por igual y ni lo han sido todos estos años estamos dispuestos

ponencia especial constituida para tratar la reforma de la ley de memoria histórica las aportaciones de todos los grupos políticos y actuar de esta manera

el horizonte dejando que el viento de la historia por fin se lleva el odio que genera también ese panteón monstruoso y que su siniestra memoria se diluya para siempre en el aroma de las jaras que perfuman eso sí el valle

ya no es tiempo de titubear es cierto ha sido mucho tiempo

con la aprobación de esta enmienda transaccional dentro de las competencias que podemos ejercer desde este parlamento a realizar lo que podemos por contribuir a la eliminación

una vez que consigamos atender a las pretensiones de los familiares y eliminar los símbolos de enaltecimiento franquista

lo que está claro con independencia de la resignificación que se haga después de tomar estas medidas es que la democracia es incompatible con el franquismo la democracia no se construye mientras tengamos monumentos

el autodenominado valle de los caídos la democracia no se construye

de las víctimas construyamos todos juntos una memoria

convivencia y diálogo contribuyendo a la prevención de la violencia

en el discurso pongamos fin al odio para que la herida deje de sangrar pero abriendo la herida para limpiarla hasta el fondo porque hasta ahora no la hemos limpiado

no se construye contra nadie no ofende a nadie sino que beneficia a toda la sociedad el valle de los caído como cualquier monumento es que

de enaltecimiento del fascismo en este caso del franquismo no puede entenderse jamás como un acto

como un acto de desmemoria y de humillación a todas las víctimas que sufrieron
la guerra civil y la dictadura muchas gracias eskerrik asko romero

ateratzeko el veintiocho de abril del año cuarenta y cinco era fusilado el dictador

en italia era detenido la víspera pasaba su primera y última noche en la cárcel y durante esa noche una locución de la radio de los partisanos indicaba en la voz de sandro pertini quien luego sería presidente de la república italiana que tenían que fusilar a

de la viga de hierro de una gasolinera en una plaza de milán durante varias horas

dictador nazi hitler se pegaba un tiro en la sien derecha

pudieran hacerse con ese cuerpo en euskadi y en españa hubo menos suerte porque el dictador franco sobrevivió treinta años

y murió en el año setenta y cinco hace dos días se cumplían sus cuarenta y tres años

haciendo las cosas bien como las había hecho es decir matar y asesinar

firmó la sentencia de muerte de cinco personas en lo que se conoció como los últimos que crímenes del franquismo y que fueron la ejecución de tres militantes del frap y de los militantes de eta

por qué he puesto el ejemplo de alemania y de italia he puesto este ejemplo porque tenemos que reconocer que no estamos haciendo nada nuevo es decir hubo dos países italia y alemania que hace más de setenta años que hicieron borrar toda la huella del fascismo y del nazismo de su vida y evidentemente no solo si paseamos por cualquier espacio público italiano o alemán nos daremos cuenta de que no hoy

ninguna escultura ninguna placa sino que también hay unas leyes que prohíben cualquier tipo de enaltecimiento del nazismo en alemania y del fascismo en italia en cualquier vía pública y volvemos aquí al principal de los asuntos y es que el valle de los caídos

al estado español es decir es parte del patrimonio nacional con lo cual todavía tiene aún más inri es decir que no es un sitio en el cual unas personas hagan lo que quieran sino que están disfrutando

y que solo sirven para enaltecer la figura de una persona que

y que como acabamos de decir con el fusilamiento de eta y frap siguió matando hasta apenas cincuenta días antes de morir él tranquilamente en la cama

que se exhumen los restos de franco del valle de los caídos que se le entregue a la familia

los entierre en el lugar privado que les dé la gana en segundo lugar también pedimos que se quiten toda la iconografía arquitectónica

a la guerra a la milicia al fascismo y a todo tipo de ideología nacional católica y en tercer lugar también

en qué es lo que va a hacer con ese lugar que como decía

también tenemos otro asunto en esta proposición que traemos hoy que es el destino de los restos

muchas veces cuando instamos a algo o a alguien parece que estamos instando a que haga algo que todavía no se ha hecho yo quiero recordar que en este caso cuando todavía no existía gogora el gobierno vasco en el año dos mil dos ya hizo un encargo

quienes eran cuántos eran y cómo estaban los restos de estos vascos después de seis años de investigación en la que solo se pudo contar con los archivos de los benedictinos que son los curas que están en la abadía del valle de los caídos

vascos y vascas enterrados en el valle de los caídos de los cuales hay cuatrocientos cincuenta que están sin identificar es decir que

detrás del asunto ya había investigado y había encargado un informe y ya tenía el informe hecho nosotros estamos completamente a favor evidentemente porque es como una segunda derrota después de fusilar a una persona y cuando ya él no lo sabe

los restos del dictador en el valle de los caídos estamos completamente de acuerdo en que se siga investigando en el que se llegué a definir quiénes son las cuatrocientos cincuenta personas cuyos restos no están identificado en cuelgamuros

su exhumación del valle de los caídos y evidentemente que vengan a euskadi para

o en el lugar donde lo deseen sus familiares y esto lo hacemos en base a dos asuntos clarísimamente

es la verdad de la memoria histórica y en segundo lugar por

por la dignidad ética de las personas que murieron en la guerra y también y ahí entran todos ustedes por la dignidad ética de quienes nos consideramos con orgullo herederos de las personas que perdieron la guerra aquí ha habido unas palabras un poco duras por parte del

en el noventa y nueve por ciento del asunto estamos todos de acuerdo entonces yo creo que

hay que decir que se puede seguir conversando entre ustedes euskal herria bildu gobierno vasco este parlamento y gogora y que no hay ninguna puerta cerrada y quiero recordar lo que he dicho antes que desde el año dos mil dos

el gobierno vasco se había interesado por el asunto y había encargado a aranzadi un informe para que dijeran quiénes y cuántos

la pega es que esto no depende de nosotros depende evidentemente del gobierno de españa nosotros desde aquí lo que hacemos es apoyar

un dedo en este tema tenemos que apoyar la decisión de las cortes generales del catorce de septiembre de este año de hace dos meses en la cual se instaba a lo que hemos pedido nosotros aquí exhumar

fascista y franquista del valle de los caído y luego evidentemente decidir qué es lo que se quiere hacer con aquella instalación besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

lehendakari consejera señorías buenos días a todos miren para que quede bien claro a mí no me gusta el valle de los caídos

no me gusta su significación y su estética y yo también apostaría por su resignificación en el marco de las leyes de la actuación en el congreso de los diputados

lo menos mi grupo se va a abstener en relación con esta iniciativa

desde nuestro punto de vista o desde mi punto de vista no se empeñan los proponentes de estas iniciativas una vez más traer a este parlamento como proposición no de ley cuestiones que básicamente a la regulación y capacidad de actuación de nuestras instituciones o por lo menos que requieren previamente otras actuaciones léase normas léase modificaciones legales para luego poder actuar no para nosotros es básico

en una iniciativa de estas características sin ser voluntaristas

que se ponen a disposición y ahora los hay y además

en el propio congreso de los diputados para poder materializar además normalmente o normativamente la inmensa mayoría de las cuestiones que ustedes proponen aquí el gobierno de españa aprobó el veinticuatro de agosto el real decreto ley diez

se modificó la ley cincuenta y dos barra dos mil siete de veintiséis de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil la dictadura la ley de memoria histórica

nadie se ha referido como elemento de importante de gestión ahora parlamentaria

septiembre acordó convalidar el citado real decreto ley y acordó asimismo su tramitación cómo qué como proyecto de ley

puede ser matizado en relación de cómo está el trámite pero y ese proyecto de ley hoy sigue en trámite de enmiendas que acaba mañana precisamente

pospuesto trece veces el trámite de enmiendas en un procedimiento de urgencia pues está claro que es posible que siga y

ese es el procedimiento el proyecto de ley la vía por la que transitar y luego desde aquí y desde las instituciones de aquí

seguir caminando todos ustedes además tienen grupo parlamentario en el congreso y todos pueden trabajar además en el marco de ese proyecto de ley para pronunciarse como ley

como declaración además sin ese ajuste legal o normativo necesario y sin efectos jurídicos

iniciativas como principal elemento sobre el que proceder con determinadas actuaciones

menciona y se refiere al valle de los caídos y a su significación y con lo que se tiene que hacer con él quince veces se alude al citado lugar en el texto del proyecto de ley así que hay un buen momento político

avanzar legalmente en el congreso de los diputados ampliar ese marco normativo y luego venir aquí y tomar las iniciativas a través

en esa significación o sea mejor ubicación que ese proyecto de ley para concretar estas pretensiones desde luego no es una proposición no de ley está claro que para llevar a cabo las pretensiones de la proposición no de ley es necesario realizar determinadas reformas normativas

vuelvo a decir tienen ese instrumento las pretensiones las peticiones que alberga el objeto de la proposición no de ley tienen además tal dimensión técnica jurídica presupuestaria incluso científica

por su complejidad el que se reflejen normas o instrumentos jurídicos muy distintos a este vuelvo a decir si no existiera

en trámite en el congreso de los diputados donde además está claro que existe una mayoría muy importante y muy cualificada

posibilidad de aprobar todos esos instrumentos que ustedes piden en esta proposición no de ley vuelvo a decir sin efectos jurídicos y ese instrumento jurídico está a su disposición bueno hacen ustedes apelación

a la colaboración con el gobierno de españa etcétera vuelvo a decir es válido pero si antes no se amplía el marco normativo hoy existente nada tendrá efectos como ustedes bien saben en fin yo quiero decirle también a la señora romero ella se ha referido

del valle de los caídos como algunos hablan de lugar de reconciliación

lo ha descartado ha dicho que no puede ser eso es decir yo le quiero decir que la propia exposición de motivos que ustedes han elaborado en relación

cincuenta y dos barra dos mil siete la propia exposición de motivos y además aludiendo

y dice y recuerda con ello debemos proceder a resignificar la función del valle de los caídos para que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional católica y convertirlo reconvertirlo

de la memoria colectiva democrática y de dignificación reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y la dictadura eso lo dicen ustedes es decir eso lo dicen ustedes y yo creo que está bien yo creo que está bien usted cree usted se desmarca de esa digo tienen que enmendar también está en fase de proyecto

ustedes mismos han dicho bien es decir desde este parlamento se podrán pedir actuaciones a las instituciones pero solo a la vista de ampliación de la normativa vigente eso eso está claro eso hay que reconocerlo así y hay esa posibilidad y está claro que el proyecto de ley en trámite es necesario reformarlo está bien claro que ese proyecto ley ese fue real decreto ley es posible y

y en su caso convertir al valle de los caídos no en una justificación para la bronca el desencuentro sino para poder convertirlo en una nueva significación de reconciliación y consenso nosotros sí que pensamos en eso que el propio la propia exposición de motivos

el debate sobre la cuestión no está aquí está en el congreso de los diputados ahora y es oportuno nosotros aquí nos abstendremos

todo el mundo lo sabe pues no somos no somos los mayores defensores de gogora desde el inicio por su concepción pero nosotros

podemos entender que sea un buen instrumento de trabajo pero para después de que esas cuestiones que hoy se cogen con alfileres y con pinzas señor hernández se concreten se valoren definitivamente en un texto legal porque es necesario que se concreten y se valoren en un texto legal y hay uno en marcha y en trámite ese será una buena oportunidad

sobre este tipo de cuestiones usted suele argumentar

que traemos iniciativas que no tienen nada que ver con las competencias que podamos tener en euskadi o bien nos dice que hay que hacer reformas legales al respecto la iniciativa que se ha acordado hoy

a las instituciones a cada una de ellas a dos gobiernos al gobierno de españa y al gobierno vasco y se dirige a cada una de ellas en los términos competenciales

que fundamentalmente en mi opinión aunque son profusos en la iniciativa y detallados son políticos son políticos y yo he defendido

ya unas cuantas veces en esta cámara que la función de un parlamento también es una función de opinión política

no de ley es una buena herramienta para que un parlamento que representa a una sociedad marque una posición política y hoy con lo que se va a aprobar el parlamento vasco en nombre de la sociedad de euskadi de la sociedad vasca

clara al respecto del valle de los caídos y todo lo que lo rodea

sobre las cuestiones de derechos humanos y sobre la cuestión a la que yo he hecho referencia sobre una cuestión de valores elementales

usted nos dice que es en el congreso donde se deben hacer estas cosas a través de una proposición de ley que ya está en marcha y que su partido con la mayoría de derechas en la mesa de aquel congreso bloquean constantemente yo no le voy a reprochar a usted eso porque sé que usted no es diputado en el congreso pero es su partido el que la bloquea

respaldadas en el parlamento europeo por diputados del partido popular en lo que tiene que ver

con el esclarecimiento de los crímenes cometidos por el franquismo que es una cuestión pendiente en españa el esclarecimiento de los crímenes cometidos por el franquismo y la asunción de responsabilidades por eso la iniciativa recoge una cosa que en mi opinión es muy importante

que pedimos una cosa tan sencilla como que se exhumen y se entreguen los restos a los familiares no pedimos solo eso la iniciativa pone que se haga con la debida tutela judicial eso es muy importante para que se haga justicia porque estamos hablando de víctimas

y yo no he hablado tampoco en mi intervención de que el valle de los caídos deba ser un lugar de conciliación

muy manida nosotros o yo al menos en mi intervención anterior sobre todo he puesto el acento en que creo o creemos o así lo entendemos nuestra coalición

tiene que ser fundamentalmente un lugar para explicar lo que pasó en este país golpe de estado militar contra el orden democrático legítimo y la imposición violenta de una dictadura brutal

para nosotros esa debería de ser en todo caso

del valle de los caídos y también el señor barrio dice que no le gusta el valle ya entiendo su expresión pero ya sabe usted que no es una cuestión de gustos es una cuestión como decía al principio de valores democráticos

hace unas semanas el señor alonso decía en esta cámara en una intervención que tuvo muy divertida y que nos gustó a todos mucho que era amigo mío

que sea mi amigo pero sí les voy a pedir hoy

en la verdadera defensa de valores democráticos y creo que deberían votar a favor de esta iniciativa

tratuagatik y sería muy sencillo resolverlo permítame leerle el apartado siete del artículo nueve de la recién ley de memoria histórica de aragón el gobierno de aragón prestará el apoyo necesario en las iniciativas de exhumación de las víctimas aragonesas que fueron inhumadas clandestina e ilegalmente sin autorización y en muchos casos sin conocimiento de sus familias en los columbarios del valle

es ley es ley esto ha sido aprobado en las cortes aragonesas y si aquí tendríamos una ley en unos términos similares

porque precisamente el gobierno ya estaría trabajando para llevar esto a cabo tendría que hacerlo de oficio y es precisamente por eso por lo que yo he introducido mi crítica y que me va a llevar a una abstención por cierto una abstención

a la que el señor barrio plantea porque pedía instrumentos legales y lo solicita aquí porque allí ya hay otros en marcha y es cierto que el real decreto habla de sacar a franco del

pero todavía no habla de cómo realizar el proceso para atraer a quienes allí fueron llevados clandestina ilegal y forzosamente como los traeremos aquí y evidentemente allí hay trabajo pero el trabajo

aquí y usted muchas veces invoca cuestiones legales e invoca cuestiones de técnica legal yo creo que para ocultar cuestiones de falta de voluntad política o de una marcada voluntad política en ciertos términos usted se puso en contra de que haya una ley de memoria histórica en esta comunidad y le acabo de leer ley de memoria histórica en aragón que permite precisamente el hacer lo que hoy estamos debatiendo aquí y yo no sé si llevaríamos a cabo ese debate y si traeríamos esa propuesta de ley cuál sería su actitud

el recurso del tribunal constitucional como ha hecho en otras ocasiones porque vuelvo a decir

o el debate legal aquí la cuestión es de actitud y la cuestión es de voluntad y me temo que su actitud es como poco

actuaciones de enaltecimiento del franquismo cierta pugna que se está llevando a cabo hoy en día dentro de la derecha española por ver quién es más fascista y que se cristalizó precisamente ayer en una votación en el senado no se sumaban ustedes a la condena del franquismo bakarrik mugitzen nau kontu bat eta da biktima

saltado el señor barrio varios pasitos a la hora de hablar

en torno a la memoria histórica o qué hacemos no no enseguida le digo de un partido que en su vida ha realizado una actuación en favor de la memoria histórica otros lo habrán hecho mejor o peor podrá ser mejorable pero que no ha hecho absolutamente nada una cosa sí en cuanto llegaron al poder mediante

paralizar todas y absolutamente todas las iniciativas que podían avalar el estado que es el competente en materia

esa propuesta se planteó en el dos mil diecisiete después de eso el partido popular junto con ciudadanos lo bloquearon

en la mesa del congreso de los diputados luego llegó el partido socialista al poder y se vio obligado a tomar otra serie de medidas con respecto al valle de los caídos

y sí es verdad que han cambiado muchas cosas desde que se interpuso esa modificación nos hemos dado

en cuanto hemos intentado sacar los restos del dictador

los fantasmas de muchos que se escudan en la abstención para seguir alimentando las dos españas

con millónes de excursiones al valle de los caídos para evitar que se

cerca de la almudena esa es la reconciliación

visto lo que opina la otra españa todavía tan viva respecto al valle de los caídos su negativa

en los votos y en las formas a que exhumemos

de allí hace pensar que efectivamente no va a ser posible aún que haya una reconciliación con respecto a ese monumento quizá

a lo mejor lo único que podemos hacer es un proceso de lavado más educacional y de tal manera que cerca se pueda hacer una especie

que explique lo que allí se hizo y a quién se le hizo que no fue por partes iguales a los mismos sino unos

se hablaba de las competencias es que no vamos a repetir otra vez

que pueda claro que este parlamento puede hacer una ley de memoria histórica vasca como se ha citado la de aragón

y la va a tener la de extremadura también figura eso pero

en el congreso de los diputados se lo he dicho pero no me quiere escuchar presentamos una modificación luego se ha creado una ponencia

estas cuestiones que dice que no pueden trabajar aquí y luego cuando traigamos la posibilidad de hacer una ley de memoria histórica vasca póngase a trabajar con nosotros para tomar una serie de medidas dentro de aquellas que entren en el ordenamiento jurídico y conforme a nuestro marco competencial

para que colabore con todas aquellas que queremos empezar a andar

el movimiento se demuestra andando podremos haber andado muy despacio el partido socialista pero hicimos la ley de memoria histórica presentamos la ley

hemos tomado medidas con el valle de los caídos y vamos a seguir tomándolas para dar la dignidad a las víctimas que no se ha dado

puramente legalistas yo entiendo que todo lo que se hace

pero yo creo que en este tema que es aparte de un tema importante un tema muy profundo dentro del sentir de la persona humana no es que haga falta como le decía al señor arzuaga voluntad porque antes de tener la voluntad hay que sentir hay que tener un sentido del

de la ética de las ganas de la reparación de las mentiras que hemos escuchado en los últimos cuarenta años respecto a la historia del treinta y seis y yo creo que eso es lo que

no es lo que siente sin tener ese sentimiento de necesidad de reparación

a los vencidos en la guerra civil y a los que les sucedemos ahora en el siglo veintiuno creo que por mucha voluntad y por muchas leyes que haya es muy difícil que se ande el camino

pero lo tengo claro es decir creo que ustedes no tienen todavía el sentido de esa justicia histórica y creo que dentro de su partido todavía hay una amplia capa de personas

más o menos lo ven con cierto gusto y no ven la justicia histórica que hacer después de todos los años que han pasado respecto al asunto de gogora

si hay culpas habrá que repartírselas en proporción directa a los miembros del consejo de dirección pero no aparte de eso tengo que decirle lo que le he dicho antes creo que en este asunto

pero pasada una vez la votación y pensando en otra vez las conversaciones

en este asunto dejáramos de ofrecer una unidad que evidentemente es la que tenemos en este asunto los cuatro partidos que hoy vamos a votar esta propuesta

gracias presidenta no sé yo creo que no me ha querido entender

que hay un marco de actuación donde podemos avanzar y donde se puede avanzar con mayorías democráticas y mayorías parlamentarias en relación con superar las cuestiones que ustedes ponen

que puede ser legal a través de un procedimiento

es decir no sé si eso es discutible o no pero yo creo que es

asumible en una posición política de un partido político que entiende ese funcionamiento político parlamentario y que yo he dicho después que a partir de esas decisiones que se tomen por mayoría y que sean leyes aquí luego podremos actuar y yo seré el primero que reconozca que tengamos que actuar y que tengamos que poner y que utilizar los métodos que tenemos a nuestro alcance como puede ser gogora o como puede ser otro es decir no

usted el primero señor hernández usted el primero porque refiriéndose a nuestro presidente

se conoce que les ha estimulado usted nosotros tenemos muy claro lo que hacemos y la consideración y el respeto de la ley

y su valor y la democracia y el planteamiento democrático en la confección de las leyes hará que nosotros tengamos que asumir lo que tengamos que asumir y yo creo que es un buen momento para ver ese planteamiento y una oportunidad

desde mi punto de vista y es que además oyéndoles a todos ustedes

parece que estamos igual que en el setenta y seis parece que estamos igual

son terribles sus discursos en la tribuna en relación con esta cuestión es decir

el que más veces habla de franco en este parlamento es el señor arzuaga

es un hooligan del recuerdo del franquismo en esta cámara porque le gusta

yo creo que hay otras formas de trabajar estas cuestiones que no es seguir buscando el enfrentamiento y muchas veces acabar con esa reconciliación de la que todos hemos hablado porque la señora romero

la reconciliación pero cómo puede usted decir eso es que ya se ha producido en términos esenciales que no se puede negar el camino que hemos recorrido los españoles y los vascos

no ha sido de planteamientos éticos en relación con el pasado no ha sido

y ahí hemos estado y ha sido una reconciliación vamos a ver señor hernández para nosotros la ley

habla de eso la ley de amnistía del setenta y siete como lo recordaba su exjefe de filas

es una de las piedras angulares de la reconciliación de la democracia de la transición

tengamos que volver a oír esas reflexiones tan críticas con lo que ha sido elemento clave es decir hemos avanzado mucho efectivamente tenemos que avanzar más

habrá cuestiones que reconocer y caminos por los que transitar y hoy

que es un instrumento jurídico en el congreso de los diputados por el que andar desde luego ahí en el proyecto de ley que está en trámite se habla de la

de franco pues bueno se puede hablar de más cuestiones se puede hablar de todas esas cuestiones

regularlas reglamentarlas y luego que organismos o instituciones como las que nosotros amparamos pues puedan hacer su trabajo también en un ámbito también de conformidad de reconciliación pero en ámbito legal y yo entiendo que ese es el elemento fundamental hoy no hemos venido aquí hablar de nuestras leyes de memorias históricas tenemos marcos legales la ley de memoria histórica que ahora

es un marco legal en el que nosotros podemos trabajar y nosotros vamos hacerlo en esa clave

a mí no me gusta nada el valle de los caídos ojala tenga una significación distinta muy pronto ojala y hay instrumentos y hay elementos para que eso pueda ser así pues jueguen ustedes pero normalmente

en el debate político parlamentario muchas gracias eskerrik asko barrio jauna eztabaida

una reparación que implica el derecho a la verdad a que el relato de la violencia vivida

sean legítimamente escuchadas desde el parlamento vasco debemos asumir nuestra responsabilidad social y política en la construcción de una sociedad que garantice el derecho a la verdad de las víctimas para ello el parlamento vasco se compromete a contribuir en la mejora de los servicios en aras de desarrollar una red de servicios de apoyo para garantizar la atención integral a las mujeres en su recuperación desde el enfoque feminista de empoderamiento y reparación

eta indarkeria mota anitzeko edozeinen aurrean los niños y las niñas que migran viajan a otros lugares en busca de oportunidades que no encuentran en su propio país otras veces los niños son forzados a desplazarse bien por causas como la pobreza la violencia

o porque se convierten en víctimas de tráfico o explotación

para las personas migrantes y refugiadas que buscan seguridad en europa

según cifras de las naciones unidas además más de seiscientos cuarenta niños y niñas han perdido la vida desde el año dos mil catorce en la misma travesía

no están certificadas ni documentadas desde la perspectiva de los niños y las niñas migrantes son sujetos de derecho y deben primar su condición

el parlamento vasco comparte con el gobierno vasco y se compromete a apoyar estatuko